la presentamos conjuntamente el partido nacionalista vasco y el partido socialista

digamos que una presentación de carácter formal porque esta es una ponencia el objetivo de la pnl es retomar una ponencia que ya en su día fue

unánime de esta cámara esto lo hicimos en mayo del año pasado posteriormente

un acuerdo de comparecencias para implicar a los agentes económicos sociales

un listado de consenso para que se participara en esos trabajos de la ponencia y como digo también fue objeto de acuerdo de todos los grupos después vino la convocatoria electoral la pandemia

pero en realidad estamos ante un acto en el que solo pretende

la constitución de esa ponencia y ponernos a trabajar sobre un listado de comparecencias ya acordado para abordar la situación

social poblacional que tiene la comarca de ayala orduña orozko arakaldo y arrankudiaga

creo que ya el debate se hizo en su día en relación a por qué había que enfrentarse a esta situación se habló de la situación de paro de la situación industria

captación de capital para inversión de la necesidad de mejorar la innovación

la pandemia ha introducido un elemento más negativo en esa situación industrial económica y social porque

en el que la caída de pedidos y la dificultad para la exportación están generando tensiones muy importantes

el desarrollo socioeconómico de la zona sobre todo del valle de ayala pero

también tienen sus situaciones particulares y también es necesario

determinadas diferencias bueno este es el objetivo de esta iniciativa y no quería

más político porque me parecería que sería aprovechar simplemente un espacio y una formulación

que creo que ya no corresponde porque este es un protagonismo compartido

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburu jaun andreok lehendakari jauna egun on bueno el señor prieto ya ha explicado esta es una ponencia que se creó

pasada hoy se reinicia el trámite se llevará la lista de comparecientes y bueno la situación que vivíamos en el diecinueve también la seguimos viviendo hoy agravada por el sector de oil and gas el sector de los tubos como ha explicado el señor prieto por tanto aurretik daukagun

legebiltzar honetan hartuko dugu neurriak adosteko en la pasada legislatura se trabajó en una ponencia que fue referencial que fue el de la margen izquierda que amplió

y a meatzaldea y se iniciaron una larga lista de medidaas en un comienzo en un plan de choque y posteriormente

interistitucional que aún se está gestando y bueno pensamos que sería muy importante llevar este éxito esta estrategia de éxito

es posible que no utilicemos exactamente el mismo patrón creo que la experiencia de esta ponencia

lecciones que pudiéramos aplicar en esta nueva experiencia por ejemplo

el ir gestando con las instituciones también trabajando de la mano de las instituciones la adopción de medidas

ayuntamientos diputaciones y gobierno los que van a trabajar en este plan de choque si es que decidimos hacer un plan de choque y la posterior

interinstitucional si es que decidimos hacerlo así pero el abonar el terreno de la cooperación antes

o del acuerdo de las conclusiones creemos que puede ser interesante

para esta legislatura una tasa de paro por debajo del diez por ciento y un peso de la industria y del sector de avanzado de servicios avanzados por encima del cuarenta por ciento

de una forma equilibrada para que tengamos un desarrollo territorial equilibrado en euskadi es tiempo ahora de iniciar la ponencia

inmediatamente a trabajar en ella con ganas

el modelo productivo hacia sectores de futuro desde los mimbres que ya existen

ni termina con la ponencia pero va a ser un hito importante en el camino eskerrik asko eskerrik asko arruabarrena jauna

reactivar investigar y atinar son acciones todas seguidas nobles y en las que van encontrar siempre a esta parlamentaria donde van a encontrar a vox

los caminos de la economía es cierto que nunca son sencillos y la tarea de la reactivación

puede ser como es el caso multicausal es obligatorio un trabajo multidisciplinar un trabajo desde el que podamos asegurarnos que los recursos que se destinen sean adecuados en tiempo

en resumen somos conscientes de la situación de su complejidad y de cómo estas han aumentado con la crisis del covid diecinueve con la pandemia

entendemos que ese debate efectivamente debía ser muy corto y muy rápido porque un tema como ya se ha dicho debatido en la legislatura anterior así yo también seré muy breve

para la reactivación de la comarca de aiala seríamos mucho más partidarios de instar al gobierno vasco a iniciar directamente la reactivación de la comarca presentar una partida presupuestaria suficiente y ponerse manos a la obra ya creo que fue napoleón el que

si quieres arreglar un problema nombra a un responsable

nombra una comisión en este caso una ponencia por tanto esta ponencia no sé qué utilidad tiene más que

quizá partidarias y a lo mejor complicar las cosas o es que quizá no tenemos claro lo que hay que hacer bien también tenemos que decir

que estaría bien que el gobierno vasco hiciera una relación de las comarcas más necesitadas se establecieran una serie de indicadores para establecer prioridades

y las desigualdades y no solo económicas que limitan los proyectos de vida de muchos ciudadanos pero vamos que nadie se preocupe porque en esta ocasión también vamos a votar a favor de la propuesta por tres razones fundamentales una porque realmente creemos que es necesario reactivar la comarca de aiala los datos económicos son

segunda porque es lo que demandan y lo que necesitan los habitantes de la comarca

y los políticos estamos a su servicio está cámara también así que no hay más que decir y tercero porque el tema

la misma propuesta ya fue aprobada por unanimidad en la anterior legislatura y por tanto esperamos que en esta ocasión también obtenga el mismo respaldo unánime de la cámara

o pequeñas diferencias partidarias de detalle o de procedimiento muchas gracias eskerrik asko gil jauna elkarrekin podemos

decía que respaldábamos la ponencia la propuesta de reactivar esta ponencia de aiaraldea y el resto de los municipios que hemos mencionado una comarca y unos municipios que están en una situación complicada no solo en el caso

especialmente y además es un acuerdo unánime de la pasada de la pasada legislatura pero pensamos que que tiene que ser bueno que tenemos que intentar hacerlo en un tiempo

en el corto plazo en cuanto a los fondos europeos yo creo que también tenemos que decir que tanto araba pero especialmente aiaraldea es una de las grandes olvidadas de la relación inicial de proyectos

puerta abierta para cambiarlo entre todos y todas yo creo que si estamos de acuerdo en esta ponencia y en algunas de las conclusiones podemos aprovecharlo ojalá además se ampliase a bueno pues al conjunto del país

con realidades diferentes entre los grandes núcleos y las zonas rurales pero creo que hay políticas que se pueden poner en marcha para fijar población

para ello y también generar política de vivienda pública

por decir muy deficiente o sea la diputación de araba va a abrir una oficina ahora y creemos que bueno pues que llega especialmente tarde eta esan den moduan ere bai garraioaren

bilborekin eta baita ere eskualde barruan el recorte ahora mismo debido al covid diecinueve en la línea cien tres de renfe

con bilbao parece que algunos de los temas se van a solucionar en febrero que tampoco es que vaya a ser demasiado pronto pero sabemos que se van a solucionar pero esa línea necesita

del gobierno del estado pero a partir del año dos mil veintiuno por parte del gobierno vasco que va asumir la transferencia en ese sentido y nada más de estas cosas son las que

decía que afrontamos una crisis sin precedentes inmediatos que todos estamos de acuerdo en considerar que era

y resulta que nuestro sistema de protección estaba preparado todos y todas insisto todos los gobiernos han introducido modificaciones de diferente calado para flexibilizar el acceso a los diferentes sistemas de protección excepto nosotros nuestra singularidad en la gestión de la crisis de la covid no debe descansar precisamente a contracorriente del resto de gobiernos en este punto miren lo ocurrido con las personas profesionales de la cultura es un ejemplo muy representativo de qué estamos haciendo

el ministerio de trabajo y economía social del gobierno del reino de españa anunció el acceso extraordinario a una prestación por desempleo de los artistas en espectáculos públicos

el gobierno vasco en cambio en paralelo anunciaba una ayuda dirigida a las personas profesionales de la cultura en la que si estos cumplían unos determinados requisitos entraban en un sorteo entraban en un sorteo para recibir una ayuda

abre un tiempo de incertidumbres un tiempo de incertidumbre para miles de familias de nuestro país meses e incluso años de incertidumbre nuestra obligación es aportarles certidumbres

pero no nos vamos a engañar no va a ser así no tenemos todas las respuestas sobre un futuro inmediato que estará

aportar algún tipo de certeza a la ciudadanía entre ellos se encuentran los ingresos

a garantizar los ingresos económicos de la ciudadanía porque no podemos seguir como hasta ahora las medidas desplegadas hasta la fecha por el gobierno no han hecho otra cosa que aumentar la incertidumbre de la ciudadanía los ingresos de una trabajadora autónoma no pueden depender de que una página web se colapse a las cuatro de la mañana ni que once horas varios minutos y segundos después de que se acabe el crédito

de un sorteo los ingresos de las familias que afrontan el cuidado de familiares y enfermos no pueden depender de primaveras que no llegan

esta imagen esta imagen sintetiza los términos de las políticas de protección desplegadas hasta la fecha por el gobierno vasco han lanzado a la ciudadanía una suerte de juegos del hambre

no podemos seguir añadiendo más incertidumbre debemos adoptar

que nuestra ciudadanía tenga la certeza de que si se encuentra en tal o cual situación verá garantizados sus ingresos es el momento de que dejemos de hacer girar las necesidades de miles de personas en torno al presupuesto para que sea el presupuesto el que gire en torno a las necesidades de las personas hau da

los propios informes elaborados por el gobierno vasco afirmaban que uno de cada cuatro hogares de la comunidad autónoma del país vasco carecía

uno de cada cuatro qué creen ustedes que ha pasado con ellos qué creen que pasará si no actuamos

cómo estamos protegiendo a nuestra ciudadanía a aquellas personas afectadas

a los datos que disponemos a fecha de hoy

ciento once mil trescientos veinte personas afectadas por erte protegidas por

mayo ciento doce mil seiscientos veintiocho personas afectadas por un erte

junio sesenta y cuatro mil setecientos doce personas afectadas por un erte

mil novecientos treinta y siete julio treinta y uno mil ciento noventa personas afectadas por un erte protegidas por la rgi novecientos siete agosto

protegidas por la rgi seiscientos setenta y ocho y septiembre dieciséis mil ochocientos cuarenta y cuatro personas afectadas

es decir nuestro sistema de protección la renta de garantía de ingresos durante los últimos meses desde que se desencadenó la pandemia y comenzaron

solo ha sido capaz de proteger al tres por ciento de las personas trabajadoras afectadas por un expediente de regulación de empleo solo

cuando al fin el gobierno decidió actuar ante esta situación y digo decidió actuar y reaccionar porque recordemos que se opusieron en mayo en la diputación permanente

articuló una ayuda que no ofrecía protección cuando esta era más necesaria porque solo iba a proteger a las personas que estuvieran en erte desde el mes de julio

quedaban fuera de esa protección excluía es decir a aquellas personas que se hubieran visto

durante esos meses gainera jaurlaritzak iragarri zuen

el gobierno vasco una vez más primero prensa y después piensa gainerako

bereziki decía al principio de mi intervención que este no era el carril de euskal herria bildu

euskal herria bildu apostó por que las certidumbres que debíamos ofrecer a la ciudadanía tenían que articularse a través de las prestaciones económicas de derecho de derecho

hemos dejado temporalmente a un lado el mínimo común múltiplo y apostábamos y hemos tratado de buscar el mínimo común denominador introducir algunas reformas en una ayuda para tratar de proteger más y proteger mejor a la ciudadanía

reformas una vez más no ha sido posible

decir una cosa los comedores sociales han vuelto a ser el centro de las vidas de muchos vascos

y nos han respondido desbordados esa es la realidad de la sociedad no de todos es cierto pero sí de una parte notable y en alza de nuestro pueblo

por lo que entendemos el enfado el notable enfado que muchos vascos tienen en la calle respecto a la clase política pero es verdad políticos los hay buenos los hay malos

tanto que hay hasta un dicho popular que no es mío que dice vale menos que la palabra de un político a dónde quiero llegar con esto que al leer el programa de gobierno euskadi en marcha ese documento lleno de buenísimas intenciones y que hará llegar la felicidad eterna a todos los vascos uno puede creer que hay algo de verdad en él pero la realidad es que es un ejercicio de puro populismo nos engañan una y otra vez mintieron y escondieron datos antes de las elecciones

pero cuál es la realidad que un gran porcentaje el dieciséis por ciento de la población trabajadora

esto quiere decir que el trabajo no es garantía de salir de la pobreza

ni llegan ni llegarán y hemos visto durante el mes de septiembre medidas que tratan de paliar esta situación

y es que señores de la izquierda trabajadora la señora tapia indicó a mediados de septiembre que la única solución era bajar sueldos para salvar empresas señora tapia para este viaje no hacen falta alforjas se llenan la boca con grandes promesas pero la realidad es que

el fácil y es que no es admisible la situación

y también somos líderes en gasto político es desolador pensar que nadie ha sido capaz de condenar el sobredimensionado gasto político por ejemplo la jornada de hoy nos cuesta a todos los vascos nueve mil noventa mil perdón noventa mil cuatrocientos euros o lo que es lo mismo el equivalente

y así todos los días desde vox apostamos por un modelo en el que se busca maximizar el ahorro respecto al gasto político creemos que el dinero de los vascos

sobre todo haciendo una moción especial a las familias numerosas uno de los colectivos más necesitados

siendo conscientes de que el objetivo de todos los grupos es buscar una fórmula para garantizar el bienestar de nuestros trabajadores décimos que no podemos dejar que el peso de la crisis recaiga siempre en las espaldas de autónomos hosteleros obreros empresarios debemos

y proyectos en los que se puedan constatar duplicidades esa es nuestra opinión muchas gracias eskerrik asko martínez andrea elkarrekin podemos

a elkarrekin podemos izquierda unida desde luego y me gustaría empezar por ahí

las ayudas puestas en marcha porque son ayudas aunque las llamemos

para las y los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo

por raciones de covid nos parecieron en su día una muy buena noticia

nos lo siguen pareciendo era una reivindicación una reclamación que pusieron sobre la mesa las centrales sindicales los sindicatos desde el minuto cero es decir

desde el mes de marzo y están vinculadas precisamente a la aprobación de esas medidas extraordinarias a las que ha hecho referencia el señor

decreto del diecisiete de marzo que entre otras muchas cosas flexibilizaba los expedientes de regulación temporal de empleo porque en las condiciones en las que estaban a través de la reforma laboral del partido popular herramienta eficaz para detener la más que previsible sangría de despidos que se nos venían encima a raíz de esta crisis

todos los grupos presentes en este parlamento y en otros que esa medida ha sido fundamental

de despidos a pesar de la situación es curioso ver en el teleberri ayer mismo datos que parece que

decían en el teleberri que en euskadi el desempleo descendía es verdad que influyen otros factores la situación que ha habido en verano etcétera pero esta situación en una crisis como la que estamos viviendo escuchar que datos de desempleo descienden no solo se mantienen

sin esas medidas las ayudas sobre las que discutimos hoy hoy no estaríamos discutiendo

en marcha esas modificaciones de los expedientes de regulación temporal empleo pero es verdad

estos expedientes de regulación temporal suponen una merma en los ingresos salariales de las y los trabajadores que se tienen que acoger a ellos que se ven afectados por estos expedientes una merma del treinta por ciento ante esto desde luego hay que habilitar herramientas para que las y los trabajadores a minimizar el impacto

reducción de los de los ingresos salariales

y porque como además ya se ha dicho los ahorros de la mayoría de las familias pues no dan para afrontar con una merma del treinta por ciento y aquí hay dos vías una vía que es la de las ayudas públicas que es sobre lo que básicamente debatimos hoy

una vía conveniente y que desde luego la saludamos y la saludamos en su día cuando a través del diálogo social se consiguió el acuerdo por el que en euskadi ahora mismo existen

aunque sea brevemente porque para elkarrekin podemos izquierda unida es la vía preferente la vía

que es la de los complementos por parte de las propias empresas algo que prevé la legislación laboral algo que es verdad que no vamos a discutir en este parlamento porque nosotros no podemos obligar a las empresas a complementar

las y los trabajadores en el seno de sus empresas que pelean los sindicatos

preferente pero es cierto que ni todas las empresas pueden complementar esos salarios ni en todas las ocasiones los sindicatos o los trabajadores tienen la fuerza suficiente para conseguir

negociar o que se acuerden esos complementos en las empresas y por lo tanto pues la administración pública también tiene en nuestra opinión una obligación a la hora de complementar esas reducciones salariales

con dinero público nosotros como decía cuando después de una posición timorata

en un primer momento respecto a complementar o poner en marcha

así lo dijimos y felicitamos a los sindicatos porque se hubiera conseguido aquel acuerdo por el que hoy en día existen estas ayudas nosotros mantenemos esta posición y además voy a decir que

un buen acuerdo sobre todo porque partía de una base que pensamos que era la correcta empezaba de abajo a arriba cubría a las y los trabajadores con los salarios

euros de salario bruto anual y por lo tanto nos parecía que eso estaba

en la buena dirección ahora bien hoy se nos trae a este parlamento una iniciativa

con la intención de mejorar y ampliar estas ayudas nosotros pensamos que cuando hay un acuerdo como el que se alcanzó y que nosotros saludamos

bueno no es sinónimo de inmejorable y yo quería dejar clara nuestra posición en ese sentido

para que nadie piense que cuando nosotros pedimos que se mejoren estas ayudas estamos criticando lo que con tanto esfuerzo les ha costado también

a los sindicatos pero es verdad que estas ayudas se pueden mejorar

original era la única referencia que hacíamos en realidad sobre la mejora de estas ayudas pensamos que

de igualdad las ayudas son para trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de carácter temporal a causa

pero se aplican desde el uno de julio cuando los trabajadores afectados por expedientes de regulación

de covid vienen desde el diecisiete de marzo y por lo tanto a nosotros no nos parece justo que una trabajadora un trabajador que se ve afectado por un expediente de este tipo

no tenga derecho a una ayuda que es específica para los afectados por estos expedientes y que en cambio una trabajadora o un trabajador que se vea afectado por el mismo tipo de expediente en el mes de agosto

a cobrar una ayuda específica para estos expedientes por eso nosotros lo que planteábamos fundamentalmente es que se adecuen estas ayudas al marco temporal de la cuestión que origina estas ayudas

estos expedientes de carácter vamos a decir excepcional desde luego estamos de acuerdo con que además como se plantea en la iniciativa original y que hemos llegado a un acuerdo con el grupo eh bildu además se puedan mejorar sobre todo hay una cuestión

acoger a ese tipo de ayudas está bien porque recogen a los salarios más precarios pero creo que nadie podrá discutir en este parlamento

donde no estamos hablando de buenos salarios y por lo tanto ahí se puede mejorar

nosotros realmente no le estamos diciendo al gobierno

que este debate va a estar encima de la mesa porque estas medidas surgieron producto de la negociación con los agentes sociales lo que le pedimos al gobierno

que ponga en marcha los mecanismos necesarios es decir hablo en nombre de mi grupo le pedimos al gobierno que lleve esa posición a esa mesa de diálogo social y que lleve esa posición a las reuniones y encuentros que tengan con los agentes

se pueden mejorar y por lo tanto nosotros es lo que pensamos que se puede hacer y es lo que le pedimos al gobierno que se haga brevemente porque se me acaba el tiempo

de duros pensamos que el único argumento real por el que se puede

de que las ayudas puedan ser mejoradas pues es de presupuesto o de dinero por eso nosotros incluíamos algo en lo que siempre damos mucho la tabarra que es la cuestión de la reforma fiscal porque sabemos que fundamentalmente son las y los trabajadores los que

la carga impositiva en este país y no lo décimos nosotros lo han dicho muchos agentes y no solo los sindicatos y por eso vamos a insistir en esto sí es un problema de monto económico vayamos a poner también las soluciones para que haya los recursos necesarios

es que no se cierre a propuestas de mejora de ayudas que son buenas que las impulse porque el gobierno puede hacerlo y debe hacerlo

bueno en estos días en numerosas declaraciones públicas los distintos

otros de la coalición partido popular ciudadanos hemos sostenido que a la vez que se aprueban nuevas restricciones para

en el ámbito sanitario de la pandemia esas medidas deben de ir acompañadas de otras medidas en el ámbito

que estas restricciones están provocando en la economía del día a día de numerosos sectores y colectivos

comerciantes autónomos empresarios en general y trabajadores que son los que están siendo afectados como digo por las consecuencias de esta crisis económica derivada de la pandemia

nuevas medidas en este caso hoy debatimos medidas dirigidas a los trabajadores afectados por los en los distintos ámbitos como todos sabemos la crisis sanitaria ha generado

la declaración del estado de alarma que ha ocasionado una merma de la reducción de la actividad empresarial con una clara repercusión en las personas trabajadoras

de sus contratos o la reducción de su jornada consideramos

instrumento precisamente además previsto en la reforma laboral aprobada por el partido popular para evitar

destrucción de empleo y la incorporación de más personas a la lista de desempleados desde el partido popular y ciudadanos consideramos que el plazo inicial de los erte fijado hasta de vigencia hasta el treinta y uno de septiembre

y en este sentido nuestro portavoz carmelo barrio presentó una iniciativa ya el veintiocho de agosto solicitando por un lado prorrogar

y por otro buscar fábulas para su ampliación en otros ámbitos particularmente a empresas del sector industrial tenemos que decir que la víspera del debate

entre el gobierno la patronal y los sindicatos

hasta el treinta y uno de enero de dos mil veintiuno este hecho motivó

sin embargo también tengo que decir que viendo el escenario en el que actualmente nos encontramos y la situación tan complicada

y trabajadores que están viendo cómo se están suspendiendo sus contratos o reduciendo sus jornadas creemos que se tienen que arbitrar

que palíen los efectos de esta crisis tanto en nuestras empresas como en los trabajadores dentro de las competencias en el ámbito autonómico se aprobó una convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo derivados del covid diecinueve por un importe de quince millónes de euros

se deben se puede sin duda hacer mucho más y en este sentido teniendo en cuenta el escenario en el que nos encontramos es necesario

nuevas medidas se nos ha repartido una enmienda de transacción alcanzada por izquierda unida y el grupo elkarrekin podemos izquierda unida y el grupo proponente

sí que es cierto que podemos tener coincidencia alguno de los puntos a los que se hace referencia y algunas cuestiones concretas pero a la vez también pues no coincidimos

también ustedes entenderán que la posición del partido popular radicalmente contraria en materia impositiva a la que ustedes defienden sí que podemos coincidir en el tema de las ayudas de estas ayudas extraordinarias que obviamente hay que prorrogarlas hay que aprobar una nueva resolución se tiene que dar cabida a que todas las solicitudes puedan ser

una crítica a este gobierno porque creemos que no está a la altura de las circunstancias de las ayudas que están necesitando las personas directamente afectadas

de sectores específicos a la vez que

hablamos de estas ayudas en concreto

cómo no el diálogo social a fin de que todas las medidas que se puedan adoptar en cuanto a la prórroga o la ampliación

se adopten también medidas específicas para afrontar la situación de las empresas trabajadores y autónomos

al gobierno vasco y en virtud de las competencias que tiene atribuidas que adopte adapte mejor dicho la resolución del ocho de julio de dos mil veinte del director general de lanbide por la que se procede a la publicación de la convocatoria de estas ayudas para las empresas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal y que se adapte

de los sectores que las están padeciendo pero por otra parte al margen de arbitrar ayudas y luego

tendremos ocasión también de debatir una iniciativa del partido popular que creemos que es necesario que este gobierno también para este gobierno mejor dicho sea una cuestión prioritaria que es la reforma del sistema vasco de empleo es la reforma de la legislación que regula

y también una reforma integral de lanbide del servicio vasco de empleo para ponerlo de una vez por todas el servicio de la empleabilidad y a la atención de las personas que están desocupadas y en este momento

que están en las listas de desempleo es necesario ese plan integral para desde luego corregir las múltiples deficiencias que presenta este servicio

cómo estos días lamentablemente hemos asistido a ver cómo funciona

con un servicio colapsado y que también ha imposibilitado tramitar las ayudas con la agilidad debida y atender las solicitudes que se estaban produciendo y también tenemos que decir que muchas de las solicitudes tampoco han podido ser atendidas

se ha acabado el dinero por lo tanto en ese sentido pedimos un esfuerzo de financiación por parte del gobierno vasco para que estas ayudas

que están en esta situación y por otra parte que los servicios encargados de tramitar estas ayudas funcionen

defenderemos nuestra enmienda porque creemos que es la más completa y sin perjuicio obviamente de que también pueda haber coincidencia

muchas gracias presidenta la pandemia de la covid diecinueve nos ha puesto a todos frente a un escenario de crisis económica y social y sabemos por experiencia que hay muchas formas de afrontar la crisis y desde el principio

nos hemos negado a que de estas salgamos con más desigualdad con una sociedad menos cohesionada o con un estado de bienestar debilitado hace una semana en este mismo salón de plenos la vicelehendakari idoia mendia

no es el momento de competir entre instituciones sino de colaborar entre nosotros para ofrecer respuestas en nuestros ámbitos de competencia

las ayudas extraordinarias a los mismos y sus prórrogas son un buen ejemplo de ello pero la importancia de estas medidas

empleada para llegar a ellas ambas han nacido

en base a las mesas de diálogo social y esto es algo muy importante porque supone un compromiso nítido de ambos gobiernos

de concertación social que tenemos que no son otras que las mesas de diálogo social la iniciativa de eh bildu deja entrever algo que ya conocemos y es que no comparte ese modelo esto viene a explicar en gran parte que su iniciativa sea en realidad una enmienda a la totalidad a los acuerdos en el seno del grupo de empleo de la mesa de diálogo social de euskadi es verdad que han hecho un intento de acercamiento pero lo cierto es que hemos chocado con algo que desde el inicio estaba ahí nuestra diferencia de modelos y eso se ve al leer su iniciativa

obvian la existencia de una mesa de diálogo social en euskadi que es la que ni más ni menos ha planteado estas medidas y obviando eso le piden al gobierno que cambie unilateralmente los acuerdos que en ese foro se han adoptado vemos que ni siquiera

en la enmienda de transacción ni una sola mención a la existencia de la mesa de diálogo que es el foro por mucho que alguno de los firmantes diga qué es lo que entiende ni una sola mención a la mesa de diálogo social no es lo que se pide en la enmienda transaccional firmada yo quiero recordar que desde que en el gobierno socialista del lehendakari patxi lópez se adoptó la decisión de recuperar

los socialistas no hemos abandonado nunca esta vía ni estando en la oposición ni estando en el gobierno

ese foro se institucionalizó con un decreto que lo situó como foro permanente de concertación con un funcionamiento reglado y que es lo que se obvia

siguiendo ese camino la vicelehendakari ha decidido fortalecerlo como ese foro de concertación de las políticas públicas en favor del empleo de calidad y los socialistas hemos asumido siempre con absoluta lealtad y convencimiento

y como entenderán hoy no va a ser la excepción y por cierto esa lealtad ese convencimiento los socialistas los tenemos tanto a los acuerdos

como los que se adoptan por la mesa de diálogo social en euskadi lo que nos sorprende sinceramente es que otros no lo hagan a eso ya llegaremos

baititugu los socialistas apoyamos en su integridad los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo social en madrid y en el grupo de empleo de diálogo social en euskadi simple y llanamente porque han dado muy buenos resultados en primer lugar porque el modelo de los erte surgido del diálogo social impulsado por el gobierno de españa

ha salvado derechos y ha salvado empresas y en segundo lugar porque

impulsada por el gobierno vasco ha permitido complementar las prestaciones públicas de las personas incluidas en un erte con una base de cotización

euros anuales y eso simple y llanamente es bueno y habrá quien piense que podría hacerse que podría haberse hecho más como estoy seguro solo hay que ver los diarios de sesiones del congreso de los diputados

que piense que el escudo social es excesivo pues bien son opiniones y opiniones tenemos todos pero más allá de las opiniones lo cierto es que gracias a esos acuerdos y la prórroga de los mismos se han salvado

en españa y se ha permitido que millónes de personas decenas de miles aquí en euskadi no acaben en el paro por lo que han demostrado que son una fórmula de éxito para salvar empleos y para compensar la pérdida de renta de las y los trabajadores más vulnerables

que las opiniones que ha expresado aquí no dejan de ser las mismas consideraciones

de esa mesa de diálogo social en euskadi y que incluso vienen a poner en duda como tradicionalmente ha venido haciendo eh bildu la propia

ahí está la diferencia de modelo ante esto yo lo que le puedo decir es que nosotros seguiremos esforzándonos en la búsqueda de acuerdos y en la concertación

y lo queremos hacer de la mano de los agentes sociales y a la espera de que la mesa de diálogo social se complete este gobierno

y la representación de los distintos sectores empresariales pero con ello tal y como recordó la vicelehendakari idoia mendia la semana pasada existe un compromiso nítido

que es la mesa de diálogo social formalizado como espacio permanente para que estos agentes participen en el diseño de las políticas públicas que afectan al empleo de calidad más allá de las diferencias que existan en la actualidad nuestro empeño es que allí participen todos los que están llamados a participar y les tengo que reconocer que cuando vimos esta iniciativa

que podría ser posible un acuerdo con podemos nos sorprendió la enmienda que acabaron presentando y aunque hemos hecho un ejercicio de aproximación por todas partes finalmente no ha sido posible el acuerdo

del mismo gobierno de españa que lideramos los socialistas y que ha impulsado que ha defendido y que ha pedido respeto para los acuerdos adoptados

se prorroguen y por eso su postura nos parece una incoherencia en sus propios términos por una razón muy simple

no podemos olvidar que lo único que hace es mejorar las condiciones que se acordaron en la mesa de diálogo social de españa para las personas con una base de cotización más baja son conscientes de la contradicción absoluta

y piden respeto que lo merece para él y para los términos en los que se alcanzó no entendemos muy bien qué es lo que les hace cambiar el criterio para el acuerdo de euskadi que precisamente

con cotizaciones más bajas les aseguro que le hemos dado muchas vueltas y seguimos sin entenderlo del pp no nos ha extrañado tanto su punto primero que se mantenga permanentemente el diálogo político y social a fin de que tales medidas cuenten con el mayor consenso y respaldo para acto seguido en el punto cuarto pedir que el gobierno vasco cambie unilateralmente lo acordado en la mesa de diálogo social de euskadi respecto a las ayudas extraordinarias

y siguiendo con vox más allá de su enmienda porque el papel lo sostiene todo yo me quedo con los hechos ustedes votaron en contra

de las subidas de las pensiones en resumen solo han apoyado dos de los veintiuno reales decretos

creo que tampoco hay mucho más que decir con todo lo cierto es que tanto

y en buena parte superadas con la aprobación del tercer acuerdo social en defensa del empleo de españa prorrogando la vigencia de los erte así como

diálogo social de euskadi para extender hasta la misma fecha el complemento a las prestaciones públicas de las personas

los socialistas seguiremos defendiendo que el diálogo social es la vía adecuada para salir concertando las medidas más eficaces para afrontar la crisis

apostando por los espacios de concertación que impulsen las políticas públicas de empleo y que se están propiciando

los socialistas apoyamos esos acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo social en madrid y aquí en euskadi porque entendemos que ambas figuras son fundamentales en la defensa del empleo durante la crisis y para terminar dado que en la enmienda se ha hablado de la rgi de las aes y la pcv

absolutamente conscientes de que la crisis económica provocada por el impacto de la covid diecinueve ha hecho que aumenten las situaciones de pobreza exclusión y riesgo este gobierno está comprometido a garantizar y reforzar las políticas sociales en especial aquellas que inciden en el ámbito la inclusión social los servicios sociales y la vivienda

como hay un punto después en el pleno dedicado a ello me remito a lo que

y ya entonces tenía una sensación de que esto no encajaba no encajaba para hacer un análisis correcto he esperado a este momento a oír su discurso y su puesta en escena siempre interesante

esto de aquella manera no en cualquier caso ya tengo también

estupendo le he escuchado atentamente y le he escuchado atentamente y ha estado contundente ha estado contundente pero quizás hoy nos ha mostrado una imagen cómo le diría una imagen menos rompedora que otras veces

sí tengo que hacer un resumen de esto y es un resumen dirigido al gobierno que ustedes lo sepan sailburu ustedes no han hecho nada y lo que han hecho está muy mal

a la parte más dispositiva más objetiva que o más técnica por decirlo así a su parte a esa parte cinco puntos

la unidad convivencial y la base reguladora la ampliación en el tiempo de estas ayudas luego el músculo financiero la dotación presupuestaria y por último lugar

bien y nosotros frente a eso presentamos un texto en tres puntos el fortalecimiento el fortalecimiento de estas ayudas

hablamos del mantenimiento en el tiempo la prórroga estamos coincidiendo dentro del marco del acuerdo de la mesa de diálogo social y en un tercer punto ya

cojo la parte estructural la retiro no es por evitar el debate porque tenemos en el último punto ese debate y también saco si le parece bien el punto cuatro para como usted dice hoy centrarnos más en este concreto debate

y nos quedan sus tres puntos porque eso en cualquier caso el punto cuatro hay una herramienta que se llama enmiendas parciales que se pueden utilizar

vendrá dotado nosotros nos centramos en el debate sus tres puntos nuestros dos puntos

yo creo que encajan perfectamente podrían encajar perfectamente otra cuestión de análisis técnico que quiero traer aquí

usted le hace diez preguntas a la sailburu diez preguntas que son estrictamente y desde mi punto de vista qué voy a decir yo impecablemente contestadas

todas todas salvo dos dos solicitudes que están pendientes

al señor lakuntza de ela en un programa de radio que dijo no saber nada de esto hombre el departamento no me lo ha dado a mí yo no se lo he pedido al departamento sino simplemente me lo he descargado que seguramente que si se lo pido me lo da el sailburu pero

me preocupa mucho que usted se olvide de esto me preocupa muchísimo que el señor lakuntza no sepa

no sé qué me preocupa más o no sabe una cuestión de unas características

volviendo a la cuestión tan cerca en lo técnico tan cerca en lo técnico aparentemente como bien ha dicho el señor rico tan cerca en lo técnico y tan lejos en el discurso

esto aumenta mi sensación inicial de que algo no encaja aquí algo no encaja y tengo mi pequeña propia teoría usted

o no quiere o a usted no le dejan llegar a un acuerdo en esta cuestión no sé lo que persigue con esta iniciativa algo perseguirá para presentarla pero de lo que no tengo la más mínima duda

que no persigue el acuerdo usted no persigue el acuerdo señor hernández la parte contratante de la segunda parte usted esta iniciativa no se entiende sin la de hace unas semanas los complementos a los erte así de claro las competencias

aquí desde la óptica de una persona trabajadora esto de las competencias la persona trabajadora dice

son uno son uno usted presenta una enmienda a las dos iniciativas nosotros hacemos un análisis sobre su enmienda

el cuantitativo a la de aquí a la de hoy tres puntos

a la de allí tres puntos a la de allí allí la de la semana pasada la de hace quince días del señor barrio que no está hoy aquí

pero ya que aprovecha ya aprovechando que hace aquella enmienda otros tres puntos pum pum pum para aquí o sea la sailburu se va con la mochila llena de deberes

lo cuantitativo lo cualitativo el calado del impulso no de lo que usted plantea de las medidas que plantea y yo cuando lo leí no daba crédito no daba crédito

usted le insta a su ministra porque se insta a todo el gobierno pero en el punto tercero le insta a su ministra a le insto ministra a seguir haciendo lo que viene haciendo

seguir haciendo lo que viene haciendo seguir

a auto auto autocomplaciente autocomplaciente parlamentariamente hablando usted

con su gobierno en madrid seguir haciendo seguir

seguir hombre trabájense un poco más no es tan difícil

insista persiga mantenga persista señora ministra algo más no creativo seguir luego tengo que hacerle la enmienda del señor casanova

seguir desde el aprecio desde el aprecio reconózcase usted soporta a un gobierno reconózcase

en el mismo momento detrás de la pancarta y en frente lo está pasando mal estoy seguro

y me queda un minutito para terminar y en resumen

al gobierno a las señoras y señores del gobierno

necesidades y tomaron medidas es obvio es objetivo tomaron medidas y creo que también hay que atender a en qué condiciones tomaron esas medidas de escenario cambiante escenario

y un escenario no solamente cambiante en lo global sino un escenario cambiante de cambio de gobierno en lo interno aun así tomaron esas medidas

voy a decir yo no pero me voy a contener un poco yo creo que lo han hecho razonablemente bien

preguntas que parece que no existen respuestas que sí existen

un dato por ello sailburu desde aquí le vamos a seguir impulsando le vamos a seguir

mila esker presidente andrea bueno empezaré con el partido socialista va a ser más difícil hablar de lo que nos ha transmitido el representante del partido nacionalista vasco el partido socialista y determinadas

primera de ellas no son los partidos agentes sociales no somos nosotros y nosotras también un agente social esa sería la primera pregunta

acaso los partidos políticos no pueden dialogar negociar y acordar elementos relativos a la protección de la clase trabajadora vasca

segunda pregunta reflexión tercera pregunta reflexión

ustedes y nosotras hubiéramos conseguido un acuerdo de algún tipo en torno a alguna mejora del programa de ayudas extraordinarias a personas

nos quieren decir que comisiones obreras o ugt se hubieran opuesto a que por ejemplo hubiéramos acordado un incremento de las cuantías de esas ayudas o su retroactividad

lamentablemente lo que hemos visto ahora es que además la mesa de diálogo social se utiliza como una excusa una coartada para no llegar a ningún tipo de acuerdo

quieran que esa sea la función de su mesa de diálogo social porque de hecho claro hoy

en el que esa fábrica de excusas de la que hablaba hace dos semanas que ha montado el gobierno para no llegar a

pues claro está empezando a producir una serie de argumentos

sorprendentes ya no es lo que recoge euskal herria bildu en sus propuestas

o lo que se deja entrever o la intencionalidad de la persona proponente

es lo que no proponemos o lo que pensamos en nuestra intimidad y claro si estiramos este argumento

claro es que generamos unas contradicciones insostenibles es decir no hay en españa una mesa de diálogo social

eso impide que el partido socialista obrero español y euskal herria bildu lleguen a acuerdos junto con los compañeros de podemos en torno a materias como la derogación de la reforma laboral

por lo tanto conviene que sinceremos este debate sinceremos este debate las cuestiones que sí se están debatiendo en esta cámara hoy sí se están debatiendo hoy son cuestiones como si esas ayudas eran retroactivas o no sobre su periodo de ampliación

sobre un incremento de las cuantías sobre que esas cuantías se ajusten a las cargas familiares o responsabilidades familiares sobre si se incrementaban los ingresos máximos

tan básicas como que quien cumpla los requisitos actuales

pues ni en esto tan básico nos han dicho ustedes que sí ni esto tan básico ni esto tan básico pues de esto estamos hablando de estas cuestiones estamos hablando

hacer una enmienda tal no no es esto lo que queremos hoy sinceramente sin estar en nuestro carril sin ubicarnos en nuestro carril

es si podíamos proteger a más del cuatro por ciento de las personas

nada más y se lo dijimos sin líneas rojas sin ninguna línea roja eso es lo que se está debatiendo aquí

teoría de signos teoría de signos significando y significante

ha hecho uso de significantes pero sin significado los significantes sirven para transmitir un significado usted no

pues tendrá una agenda muy ocupada pero claro me ha empezado a hablar de las preguntas que yo había trasladado a la consejera de los quince mil expedientes yo sé que ustedes tienen una especie de obsesión con nuestro compañero casanova

me ha empezado a hablar de las preguntas en torno a las ayudas a las personas autónomas no de las preguntas que realizó en torno a estas cuestiones que son seis que no son diez que no son las personas autónomas que no son quince mil

y por tanto pues como no hay significado tras el significante pues poco puedo debatir con usted eskerrik asko

porque creo que la mayoría de parlamentarias y parlamentarios no han entendido nada de su intervención

creo que en la parte en la que usted se ha referido a mi grupo parlamentario lo que ha hecho ha sido hablar de una enmienda que hicimos a una propuesta del partido popular hace varias semanas

para no hablar sobre la cuestión que discutíamos hoy y sobre cuál era nuestra posición sobre

hablo yo del gobierno de españa el punto tres que ha hecho usted referencia

en nuestra enmienda pero bueno ya me explicará usted en su segunda intervención para nosotros lo importante de este debate y lo sustancial de este debate creo que se ha dado con el partido socialista y con el señor rico

reconozco que hemos tenido un debate no me refiero a hoy sino durante estos días previos y hemos hecho un intento para acercar posturas

hacía referencia sobre la puesta en valor o no de la mesa de diálogo social y sobre que en la transacción a la que hemos llegado con eh bildu obviamos esa cuestión no la incluimos es cierto

que no se incluya no quiere decir nada

que nosotros estábamos dispuestos a firmar una transacción donde explícitamente se hiciese ese reconocimiento a la mesa de diálogo social y al acuerdo concreto sobre las ayudas

llegar a un acuerdo en esos términos con ustedes sí pero hacía falta algo más para nuestro grupo

que un espaldarazo a la mesa de diálogo social porque desde luego nosotros no compartimos esa visión que

en españa y aquí nosotros respetamos las mesas de diálogo social

nuestra posición es y ha sido toda la vida la de mi coalición

con los acuerdos lo décimos y si no estamos de acuerdo desde el máximo respeto también lo podemos decir y lo décimos y lo hemos dicho en ocasiones

sindicatos como el mío comisiones obreras al que estoy muy orgulloso

una organización política y tenemos opinión

nosotros hemos dicho lo dijimos en julio y lo hemos dicho hoy a nosotros nos parece un buen acuerdo no solo que lo respetemos nos parece un buen acuerdo pero vuelvo a repetir lo que he dicho en mi primera intervención para elkarrekin podemos e izquierda unida

no es sinónimo de inmejorable y por lo tanto nosotros pensamos que si hay propuestas sobre la mesa en un parlamento para mejorar estas ayudas

para nada es una falta de respeto a los acuerdos en la mesa de diálogo social porque además en lo que se está proponiendo aquí no hay nada que vaya en contra de ese acuerdo son todo posiciones de mejora en lo que tiene que ver

y a nosotros en cambio lo que nos da la sensación es que algunos se parapetan o utilizan el diálogo social para intentar evitar debates o para intentar sustraer debates a un parlamento miren los sindicatos

y nosotros estamos de acuerdo y además es algo que siempre hemos revindicado que el gobierno hable con ellos en el diálogo social de muchas cosas por ejemplo también de la renta de garantía de ingresos creo que el señor

que si ojalá llegasen a un acuerdo sobre esa cuestión en esa mesa aquí se ha acabado el debate no vamos a debatir en un parlamento legislativo sobre la reforma de la renta de garantía ingresos

a nosotros nos parece que eso es secuestrar al parlamento el debate no se trata de faltar al diálogo social

no es faltar al diálogo social y nosotros esto lo vamos a defender además muchas de las cuestiones que planteamos la van a defender los sindicatos precisamente en ese diálogo social

participa el gobierno verdad nosotros no participamos el gobierno participa

el parlamento expresarle al gobierno

el parlamento que es la posición que el gobierno tiene que llevar a esas negociaciones es eso

no es que acaso no se posicionó el lehendakari después de un momento inicial de dudas

a a estas se estaba saltando el diálogo social no señor rico

creo que sus socios de gobierno no como demostraron la legislatura anterior

propuestas concretas en relación a ayudas y ponerle deberes al gobierno y sobre todo cuando estamos viendo que esas ayudas están siendo absolutamente insuficientes y que este gobierno no está a la altura de las circunstancias pero quiero también hoy y lamento que no esté el lehendakari me imagino que la consejera y la vicelehendakari

creo que también es el momento ya de que el lehendakari de todos los vascos tenga la deferencia en el escenario tan complicado que estamos viviendo

restrictivo creo que el lehendakari debería de tener la deferencia de convocar ya de forma inmediata a los grupos con representación parlamentaria creo que estamos en un escenario como decía complicado se están adoptando medidas

que no autoriza la limitación a seis personas que era una de las medidas que se

hoy a la tarde se vuelve a reunir el órgano interinstitucional de coordinación de las medidas que se deben adoptar para hacer frente a este escenario como decía tan complicado

esta tarde también se reúne el consejo interterritorial el órgano en donde está el gobierno central y los consejeros de las distintas comunidades autónomas y por lo tanto creo que yo creo que ya es hora de que el lehendakari al margen

para hablar de no solo de la pandemia de las consecuencias en el ámbito económico y social

creemos y lo quiero decir así claro desde la coalición partido popular ciudadanos que

de llamar a los partidos políticos con representación parlamentaria para tratar el escenario tan complicado que estamos viviendo

y obviamente tener una transparencia absoluta en relación a los representantes de la sociedad vasca nosotros vamos a adoptar una actitud absolutamente

quiero decir que vamos a apoyar al gobierno en todos aquellos aspectos

órganos técnicos por expertos científicos y

también tenemos que decir como hoy es el debate que estamos teniendo que se tienen que arbitrar todas aquellas medidas que sean necesarias para ayudar a los colectivos

que hacer en este momento complicado pero espero señora vicelehendakari que usted le traslade esta necesidad de que reúna de forma inmediata ya a los partidos con representación

somos los representantes al final también de la ciudadanía besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea

gracias señora presidenta decía el representante de bildu que sinceremos el debate yo no he hecho otra cosa igual usted hasta el segundo punto no lo no lo ha hecho o incluso igual no lo ha hecho todavía yo no he hecho otra cosa

no le puede extrañar porque es que es la postura que hemos venido defendiendo en este parlamento se lo he dicho desde el principio durante

y desde el gobierno por lo tanto yo no yo no entiendo que que a usted le pueda extrañar y seguiré luego con usted pero voy a empezar

por eso lo que no entiendo es cómo ha llegado a esta enmienda eso es lo que no podemos entender

yo le diré que creo que se han dejado arrastrar por eh bildu que ustedes nunca hubieran presentado esta iniciativa porque si de verdad creen en el diálogo social

emanados del diálogo social esta enmienda transaccional lo que viene a decir a los sindicatos es quítense ustedes que nosotros somos más listos eso no es diálogo social usted se imagina ir adonde la ministra de su partido

esto que habéis metido en el tercer acuerdo de defensa del empleo en españa que vamos a cambiarlo creo que sale del despacho pero rápidamente es que el acuerdo y las mesas de diálogo social son organismos serios

en el diálogo social si uno cree en la mesa de diálogo social tendrá que defender los acuerdos emanados de ese órgano venir aquí a decir

que es lo que están diciendo es dinamitar el diálogo social

dinamitar desde la representación del gobierno el diálogo social

a sindicatos y a empresarios esa la razón es que no entendemos cómo han podido llegar

enmienda transaccional creemos que es una contradicción manifiesta y de verdad creo que ustedes creen en ese diálogo social y no voy a ahondar más porque el objetivo créanme es llegar a acuerdos y espero llegar cuanto antes a acuerdos porque lo que es inexplicable es que acordemos en españa y aquí les de vértigo con respecto a eh bildu me ha dicho que me hacía tres preguntas yo ha apuntado dos creo que hay una tercera que se le quedado en el tintero usted me hace preguntas y yo le voy a hacer una consideración la primera no son los partidos políticos agentes sí yo ya sé que usted la constitución española igual no me gusta mire artículo seis y artículo siete uno partidos políticos otro

más tiempo dos si hubiéramos conseguido un acuerdo aquí

se lo vuelvo a decir se lo he dicho a los de podemos es no entender nada es no entender la mesa de diálogo social es no entender el funcionamiento y es violentar los acuerdos y en este caso no como en el caso de podemos creo que esa era su intención

no es porque yo me pare a pensar qué piensa usted por las noches no es porque lo han expresado continuamente en este parlamento

y a que en la mesa de diálogo social se sienten todos los agentes que están llamados a sentarse pero hombre no me diga que es que interpretamos sueños no

ni una sola mención a la mesa de diálogo social cuando saben que este acuerdo que pretenden enmendar ha salido de ahí y ni siquiera en la transacción se redimen de ese pecado

y la consideración que le voy a hacer yo creo que usted no entendió muy bien

sino de colaborar usted hoy nos ha sacado unas tablas confrontando personas protegidas

que no súmelas no las ponga confrontadas súmelas esa es la protección

el escudo social que hemos conseguido conjuntamente gobierno de españa y gobierno vasco y por cierto la consideración creo que va a tener que llamar usted

no le va bien si usted me está diciendo que septiembre había mil seiscientos noventa y tres perceptores de rgi más que en marzo lo que ha dicho

sume las tablas no las contraponga yo entiendo que a usted por su ámbito

el escudo que estamos desarrollando para los trabajadores y trabajadoras se hace aquí pero también se hace en el gobierno de españa

han sido importantísimos para decenas de miles de ciudadanos de euskadi que han hecho por ejemplo que no tengan que recurrir
nada más y muchas gracias eskerrik asko rico jauna

para que no se pierda con un planito que incluye su enmienda

y encima me ha venido lo tiene lo tiene en el móvil y además me ha hecho recordar otra cuestión que no le había dicho antes bueno ahora relacionado a estas cuestiones le decía ya tenemos algunas me preocupa ya tenemos algunos temas encima de la mesa a los que hay que dar solución desde la responsabilidad

y el fondo de compensación de víctimas del amianto qué va a hacer qué va a hacer ah vale

y en ese whatsapp tiene su enmienda y puede irse al punto dosc

en la cual les ponía deberes al gobierno vasco que lo había olvidado pero ahora me ha venido y lo he apuntado aquí a ver

mírelo el gobierno vasco no tiene entrada en esa cuestión pero también también nos insta a las fuerzas

nosotros hemos considerado siempre como esenciales los presupuestos propios y entendemos que donde gobiernan otras formaciones políticas así lo entiendan también nosotros queremos nuestros presupuestos entendemos que ustedes quieran sus presupuestos perfecto pero usted no me inste

pero usted no me inste cualquiera de su grupo de acuerdo pero

tampoco me inste usted señor martínez a apoyar los presupuestos generales del estado

luego el señor hernández y puede seguir el debate usted no me inste usted no me inste porque entonces le leo su intervención por separado aquí

por separado de su grupo usted no me inste usted predique con el ejemplo y lo va a poder hacer dentro de poco además de acuerdo esa era una cuestión que ya se me había olvidado de su enmienda que ahí la tiene

he hecho referencia además hemos pactado yo creo que en cantidad de ocasiones

a una iniciativa suya que tengo que enmendar e iba a poner seguir

hernández pero al final he querido ser un poco más creativo ya la verá el señor casanova diez barra seis efectivamente tiene razón diez barra seis

y ya lo veo porque como yo le respeto vengo aquí a ver lo que usted me dice hasta el último momento diez barra seis diez preguntas y seis preguntas

son de ayudas y las señoras y señores de este gobierno están respondiendo con esas ayudas cosa que usted negaba la mayor al principio de su intervención diez no diez diez más seis

la clase le afectó la clase siempre es bueno aprender que me aceptase una pequeña a mí también si le parece bien y desde la humildad del alumno pero aplicado y con espíritu crítico derecho político de primero yo soy del plan antiguo derecho político ahora ya constitucional no derecho político

me encantaba la teoría del poder y en concreto el poder de influencia

la posibilidad de influir en un poder más grande desde un poder más pequeño las necesidades que el análisis de las necesidades que tiene que hacer este

sobre las necesidades del otro para influir

con su planteamiento de todo o nada no le ha cogido el punto a la herramienta no le ha cogido el punto a la herramienta no influye no influye le veo que no influye presenta

de que le genera frustración me da la sensación de que le genera frustración

es un poco solo que tengo una duda no sé si la frustración es la de un actor

y viendo el gran número de afectados y las personas que han fallecido que representan el treinta y seis por ciento del total de fallecidos el gobierno ha adoptado algunas decisiones pero sí que tenemos que decir señora consejera que nosotros entendemos que han llegado tarde que ha faltado liderazgo y que ha faltado también

apoyando a las instituciones forales en muchas de las decisiones que ellas han tenido que tomar no solo las diputaciones forales sino especialmente también los centros

una en el mes de septiembre como es un protocolo específico para los centros residenciales y también hemos conocido recientemente que ustedes han

para que coordine todo lo que tiene que ver con el espacio sociosanitario nosotros creemos que estas medidas pueden estar bien este protocolo veremos cómo se pone en marcha

y también veremos esta figura que va a coordinar

si sirve para dar un impulso y sobre todo desarrollar este espacio en todos aquellos ámbitos que a día de hoy

forales en lo que es la gestión de la crisis sanitaria en las residencias no era la acertada han faltado test ha faltado material de protección a los profesionales

señor lehendakari señores consejeros señora consejera responsable

claros y pautas de actuación concretas en lo que tiene que ver con tratar las medidas que se tenían que poner en marcha

para adoptar decisiones de cara al futuro es necesario tener una foto real de lo que ha sucedido y aprender de los errores y tratar de subsanarlos

baliabide gehiago edukiko ditugu también consideramos que han aflorado deficiencias que existían

residencias en cómo eran tratados y atendidos nuestros mayores es decir ciertos problemas estructurales que estaban ahí y que no habían aflorado del todo y que han podido aflorar ahora cuando ha aparecido desgraciadamente esta pandemia como decía con un número importante de contagios y de fallecidos en

del país vasco por lo tanto podemos decir que las residencias han sido focos de contagio y

han sido no solo los focos de contagio más importantes sino que por desgracia como decía se ha llevado un importante número de fallecimientos también tenemos que señalar que en la comunidad autónoma del país vasco se ha

unos servicios sociales de vanguardia hemos sido pioneros hemos sido ejemplo en estas cuestiones en muchos aspectos y lamentamos

algo común lo que ha pasado en las residencias pero nosotros aquí

precisamente por estar en esa mejor situación

en cuanto a la disponibilidad de recursos en cuanto al desarrollo del propio sistema vasco de servicios sociales también esperamos que se podía gestionar

en este sentido el grupo popular creyó conveniente presentar una proposición no de ley para que tratara estas cuestiones que voy a pasar a explicar rápidamente pedimos al gobierno vasco que realice un proceso de evaluación

con el objetivo de analizar las deficiencias o problemas que han existido y que especialmente se han puesto de manifiesto en esta pandemia y luego así

tras tener esa foto real de la situación de los centros residenciales

para la prestación de un servicio que se ajuste a las necesidades de las personas usuarias y sus familias por otra parte vamos a pedir y volvemos a instar al gobierno creo que es algo reiterativo que hacemos todos los grupos en todos los debates que estamos teniendo sobre esta cuestión

el famoso decreto de centros residenciales ese decreto que llegó tarde llego mal incluso con advertencias de los propios órganos que elaboraron informes para la aprobación de este decreto y en ese sentido

esos déficits que presentaba este decreto sí que consideramos

un acuerdo parlamentario creo que el último fue la aprobación de una enmienda del partido popular sobre esta cuestión que tuvo los votos del partido

que se modificará este decreto de centros residenciales creemos que también ya de una vez por todas

es que realice las labores de alta inspección pertinentes para

o establecer los mecanismos de control y de coordinación que sean necesarios con las diputaciones forales para que se ejerzan las competencias encomendadas

de gobierno del partido nacionalista vasco y del partido socialista que es todo lo que tiene que ver con el espacio sociosanitario

debidamente está previsto elaborar el segundo plan estratégico de servicios sociales está también previsto culminar la cartera del servicio vasco de servicios sociales en lo referido a las personas mayores y también un nuevo modelo integral de actuación sociosanitaria pero también estas eran previsiones que se contemplaron en el programa de gobierno

materia concreta del espacio sociosanitario deja bastante que desear y por eso señor lehendakari señores miembros del gobierno señora consejera esperemos que esta este desarrollo y el desarrollar la estrategia o incluso elaborar una nueva estrategia en relación al espacio sociosanitario tiene que ser una absoluta otra cosa otra cuestión que tiene que ver también con el espacio sociosanitario es el gasto sanitario que acarrean las instituciones forales en que incurren las instituciones forales y cumplimiento del decreto de cartera también yo creo que es hora que se cuantifique y asuma ese gasto sanitario que en el caso de álava es muy evidente que no ha asumido el gobierno vasco por todo ello creemos necesario hoy también abrir este debate en relación al análisis del modelo de residencias que tenemos tener una foto fija de cuál es la situación dónde han estado los fallos

tomar las medidas que sean necesarias sé que como decía la consejera y su departamento están adoptando algunas medidas pero sin duda alguna bueno pues esas medidas vamos a también analizar si dan resultado y en cualquier caso también creemos

y ha habido cierta improvisación y falta de criterios certeros dirigidos

instituciones por parte del gobierno vasco y especialmente a los centros que prestan servicios a las personas mayores como son los centros residenciales en relación a la enmienda

que se ha presentado bueno al margen de alguna cuestión en la que podríamos introducir algún matiz bueno

de coincidencia y en ese sentido obviamente no nos vamos a oponer porque creo que también hablan claramente de realizar un proceso de evaluación del modelo residencial hablan del famoso decreto tantas veces en el que le hemos instado al gobierno que lo remita a esta cámara

y habla también del decreto de la cartera de servicios sanitarios por lo tanto creemos que también son cuestiones oportunas que se han introducido en este debate y finalmente pues con la enmienda de los grupos que apoyan al gobierno que me imagino que otra vez es la que saldrá

en esta legislatura del partido nacionalista vasco y el partido socialista a mí desde luego no se ha dirigido ninguno de sus portavoces por lo que entiendo que tampoco han querido ensanchar

pues han querido seguir como decía buscando un acuerdo más amplio que entiendo que era la intención inicial del señor lehendakari cuando hablaba de ensanchar acuerdos de país pero

esos acuerdos no se ensanchan y que simplemente se limitan ustedes

en el que no vemos y planteamientos en los que no vemos ningún tipo de autocrítica y en el que simplemente plantean seguir con las políticas

pues a nuestro juicio son insuficientes y se podría mucho más hacer en esta cuestión

bueno no apoyaremos obviamente su enmienda y sobre todo teniendo en cuenta que ustedes tampoco han tenido

de dirigirse a nosotros planteando ninguna propuesta en este sentido besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea

en la comunidad autónoma del país vasco entonces en mi turno de réplica manifesté la sincera frustración y desazón que me producía el previsible resultado de aquel debate a tal fin

rompí una hoja aquel gesto revolvió de sobremanera la bancada del principal partido del gobierno y después también

como por cierto no revolvió no lo hizo el testimonio que leí en esta tribuna el testimonio de carmen aquella directora de una pequeña residencia que expresaba su dolor por el fallecimiento de eugenia

solo recordarles que es importante distinguir entre significado y significante no diré

resultado un desenlace previsiblemente similar

caso a las recomendaciones del señor aiartza básicamente porque prefiero seguir

optimismo de la voluntad beraz heldu diezaiogun gaiari

gehiago ari dira zentro horietan lanean decía la asesoría jurídica de la dirección de servicios del propio departamento de empleo y políticas sociales sobre el decreto lo siguiente

no cabe sino reiterar lo ya mencionado al comienzo del presente informe en cuanto a la necesidad de contar con un fundamento técnico que permita analizar la razonabilidad

es decir se había regulado el cuidado diario de miles de dependientes y las condiciones laborales de miles de trabajadoras sin ningún fundamento técnico

corremos el riesgo de tener residencias arquitectónicamente maravillosas pero escasas del input fundamental para garantizar la calidad asistencial recursos humanos

ni ocupados un decreto que adolecía de múltiples

de hecho la comisión jurídica asesora de euskadi trata en su dictamen sobre el decreto de abro comillas desentrañar sus posibles significados cierro comillas

pero con un contenido más que discutible en aspectos fundamentales sensibilidad

es decir se incrementaba el número de palabras del texto mientras se reducía el tiempo de atención que recibían las personas y

residentes sino con horas de cuidado ni preocupados ni ocupados al igual que ocurría en el decreto anterior en este texto también

veinte años después en dos únicos perfiles

a este respecto el tercer sector social también manifestaba lo siguiente negar que los perfiles atendidos en dos mil diecisiete poco tienen que ver con la realidad de mil novecientos noventa y ocho

una desconexión total con la actual configuración de las residencias desconexión total con la realidad de la creciente dificultad de atención

de las más de dieciocho mil personas dependientes atendidas en los centros residenciales

el setenta y cinco por ciento de las plazas en las residencias vascas deberán ser individuales en dos años baina gezurra zen

tan poca preocupación ocupaciones llegó el cuidado de las más de dieciocho mil personas atendidas

realizaba la siguiente reflexión sobre el decreto se tiene la impresión de que se ha traído al texto articulado el contenido de los anexos del decreto de mil novecientos noventa y ocho

buena muestra de ello es la titulación de los párrafos los párrafos deben fijar una idea en una oración completa cosa que no sucede

decía leo mcgarry el jefe de gabinete del presidente bartlet en

que hay dos cosas en el mundo que nunca quieres que la gente vea cómo las haces

nahikoa izan dela uste dut qué explicación encuentra a todo lo anterior todo ese despropósito en torno a cómo regulamos el cuidado de dieciocho mil personas ni preocupados ni ocupados

en realidad reconozco que no he sido del todo justo

pero por la incidencia económica de cualquier medida que se adoptase y todo lo anterior desgraciadamente se resume en eso limitar

en eso consiste todo en limitar la inversión que hace este país en el cuidado de las personas mayores así se aplica este decreto y no lo digo yo

voy a leer un párrafo la atención a personas mayores dependientes es uno de los retos de país

y por lo tanto deberá ponderarse de manera adecuada el establecimiento de nuevas obligaciones con el objetivo de garantizar un correcto equilibrio económico

emplace decía por cuarta vez por cuarta vez en un año para la revisión del decreto regulador de centros residenciales para personas

genérico genérico al que si bien al principio

después se sumaron entusiastamente y es que ya lo explicó la portavoz del pnv en el último debate que mantuvimos hablamos de revisión

por tres fases primero es ridiculizada segundo

en el caso de los grupos del gobierno habría que corregir al filósofo alemán o matizarlo

y tercero es aceptada pero vaciada de contenido efectivo en definitiva

no es tiempo de emplazamientos genéricos no se trata de acordar textos para después

es tiempo de actuar no nos hagamos trampas al solitario no estamos hablando de un servicio público accesorio

personas de cómo pasan los últimos años de su vida de cómo son atendidos cuidados considerados y tratados

o se les da de comer del tiempo que una cuidadora

así que dejemos a un lado circunloquios por favor

presidenta hoy debatimos de nuevo del modelo residencial en la comunidad autónoma vasca ya hemos señalado tanto

que la pandemia ha puesto de manifiesto con mayor intensidad encima de la mesa un cuestionamiento del funcionamiento del sistema de cuidados en su conjunto a nivel estatal el inicio de en el inicio de esta legislatura la en se ha presentado

una enmienda presentada por el grupo elkarrekin podemos sobre la creación de una ponencia del sistema de cuidados en el pleno del uno de octubre

eh bildu sobre la preparación de estos centros residenciales para mayores ante la segunda

el ocho de octubre y donde se aprobó en el pleno la enmienda a la totalidad presentada por el grupo nacionalista vasco y socialista vasco y la tercera

que en un primer momento fue rechazada por la mesa del parlamento reiterativa pero que ante el recurso presentado por el grupo popular y ciudadanos se admitió a trámite pero aunque se ha cambiado un poco

en realidad nos encontramos dentro de la misma con propuestas muy similares a las que aparecían en la iniciativa ya debatida el ocho de octubre de ahí que el grupo nacionalista vasco y el grupo socialista presentamos entró esta iniciativa la misma enmienda a la totalidad que habíamos presentado con la iniciativa debatida el pasado ocho de octubre y aportamos los argumentos que a dicha decisión nosotros entendemos el interés de todos los grupos por presentar iniciativas en esta materia dado que las residencias de mayores

pero al presentarse todas a primeros de septiembre han coincidido en sus planteamientos y no han sido acumuladas

vamos a poder aportar más habiendo transcurrido solo trece días

debate no es que no busquemos el acuerdo señora garrido dice usted nadie se ha dirigido a nosotros hombre la iniciativa es suya

grupos a ver si se puede llegar a un acuerdo la que no ha llamado a nadie ha sido usted que es la que ha presentado la iniciativa desde luego nosotros no lo hemos hecho porque veíamos que la iniciativa era prácticamente

debatir ya el mismo ocho de octubre y por eso nosotros como ya he dicho habíamos hecho el mismo planteamiento de enmienda a la totalidad que ya así se aprobó por cierto como he dicho ese mismo ocho de octubre

en ese debate que los socialistas vascos considerábamos que debemos de seguir construyendo lo común los servicios públicos como garantía fundamental

y por eso dentro del acuerdo de gobierno hemos dado una gran importancia a ello lo expuse en el anterior pleno y lo voy

a reiterar ahora las personas son el elemento fundamental del compromiso político de la acción

el compromiso del gobierno vasco es consolidar y reforzar los servicios públicos de salud y educación y garantizar todas las políticas

de la sociedad vasca el país vasco ha sido una comunidad pionera en la puesta en marcha de estas políticas de inclusión en la lucha contra la pobreza

y los avances producidos han sido importantes y somos conscientes de que abordamos en este momento un período crítico también por

que sufrimos derivados de la pandemia por eso en el acuerdo de gobierno manifestamos nuestro compromiso por avanzar en la eliminación y lograr una sociedad cada vez más justa equitativa y solidaria sin dejar a nadie atrás y para dar respuesta a este compromiso el gobierno vasco señala el acuerdo que va a garantizar y reforzar las políticas sociales

y los servicios sociales y la vivienda

atendiendo el enfoque comunitario y a los principios de calidad innovación y nuevo equilibrio y para ello se procederá a elaborar

con el objeto de garantizar las prestaciones de los servicios contemplados en el decreto de cartera de servicios sociales planteamos evaluar y culminar la cartera de prestaciones del sistema vasco de sociales y dentro del acuerdo del gobierno nos comprometemos a adecuar el decreto que regula los centros residenciales aprobamos también en el pleno como he indicado del ocho de octubre la reiteración

compromiso y así mismo se señala que se realizará un seguimiento de la inversión de la pirámide de atención y se planificará una estrategia integral potenciando los servicios a las personas que residen en su domicilio habitual para garantizarles la plena autonomía vital

no deseada existe el compromiso de potenciar los servicios sociales

la atención a las personas mayores en su domicilio y se reforzarán los programas de respiro de las personas cuidadoras en definitiva se va a impulsar un nuevo

y coordinado con la red primaria de asistencia sanitaria para las personas

en definitiva el gobierno vasco está realizando es un trabajo importante en estos momentos como he señalado y se recoge dentro del acuerdo de gobierno próximamente el próximo lunes podremos escuchar a la consejera de políticas sociales nos expondrá la señora artolazabal nos expondrá todas las líneas estratégicas

del lunes y podremos profundizar mucho más en todos esos compromisos por ello y en esta ocasión

estuvimos debatiendo y acordamos en el pleno del ocho de octubre nosotros vamos a volver a defender también

socialista que como he indicado coincidía y recoge ese mismo compromiso

revisión del decreto ciento veintiséis barra dos mil diecinueve de centros residenciales

en colaboración con las diputaciones el plan de contingencia sociosanitario general elaborado a fin de coordinar y planificar los recursos

y a que se impulse ese modelo integral de atención sociosanitaria y coordinada con la red primaria de sanitaria y social para personas mayores

batzuen aldetik hori pasetea gure izenez el famoso cuanto peor mejor

la adecuación e impulso de medios para poder responder adecuadamente a la realidad que estamos viviendo y así se está haciendo

las instituciones vascas han tomado decisiones que han tenido consecuencias positivas

sobran adivinos solo se acierta o se equivoca el que toma decisiones el que no pues no

entendemos que toca hacer un planteamiento de cuidados a largo plazo

es por ello que hay nuevos desafíos y retos que hay que abordar y en esa tarea están nuestras instituciones si la persona mayor se quiere quedar en su domicilio

esta autonomía mediante apoyos y ofrecer alternativas al domicilio acordes a los proyectos de vida deseos y necesidades de las personas mayores en cambio si la persona tiene más necesidad de cuidados y necesita una residencia

aunque como viene siendo habitual de este debate va a salir más bien poco desde luego nada concreto y que de verdad aporte algo bueno a quienes viven en residencias a quienes requieren atención sanitaria y social coordinada

en las residencias para personas mayores del país vasco vemos también los resultados de la deficiente gestión realizada por las diferentes administraciones en esta crisis sanitaria

el gobierno vasco va improvisando medidas sin un guion claro sin un objetivo preciso más allá del de vigilar los contagios

siete meses después de que comenzara una pandemia que ha dejado más de setecientos personas residenciadas fallecidas en nuestra comunidad autónoma claro que hace falta un análisis en profundidad de la situación en la que se encuentran nuestras residencias

también con la mejora laboral de quienes trabajan en ellas y la pregunta es por qué no se ha hecho hasta la fecha por qué la inspección

a qué están esperando en el gobierno vasco en las diputaciones quizás a la tercera ola y la urgencia es evidente personas residenciadas que requieren atención prioritaria

personas a las que apenas pueden ver a las que ni se acercan para minimizar el riesgo de contagios profesionales que trabajan en residencias de mayores en condiciones muy precarias

todas sobrepasadas por la irrupción de un virus terrible profesionales expuestos también al virus y equipos de dirección sobrepasados por una triste realidad

ese plan que ya hemos renunciado a esperar por cierto un plan para todas las residencias públicas con plazas concertadas y también privadas por otro lado llevo escuchando a responsables de diferentes instituciones del gobierno vasco y de las diputaciones anunciando la pronta llegada

ese marco de colaboración en el que prestar la atención sanitaria y social coordinada que requiera cualquier persona pero la realidad es así hace muy pocos días un medio de comunicación

dentro de la consejería de salud una persona encargada de coordinar atención sanitaria y atención social de hecho

que certificaba que cada cual se centra en su ámbito de actuación y apenas colaboran entre ellos profesionales sanitarios a asuntos sanitarios

este es el escenario en año dos mil veinte y lo es desde hace décadas así el espacio sociosanitario se ha convertido en un objeto inalcanzable algo irreal necesario pero irreal

bildu profundiza en algo más en el problema aunque da la sensación de que jamás se acuerdan de las residencias privadas

seguir haciendo seguir insistiendo avanzar hacia planes integrales ese formato de rodillo que está explotando desde el día uno

evitando cualquier atisbo de autocrítica y el pnv ostenta la responsabilidad en este ámbito de gobierno y en las tres diputaciones eskerrik asko martínez andrea

y de lo que les voy a hablar les va a resonar

nace de la necesidad de comprender beraz

bildu zituen eta leku horiek hobeto ulertzeko balio izan zioten arrugas nos acerca a una realidad ineludible la de las residencias

produce cierta angustia pues nos coloca ante un espejo que nos hace mirar hacia dentro vemos que en los últimos años de una vida los de la vejez son años donde las personas cargan principalmente con tres cosas sus recuerdos la soledad y las enfermedades que las debilitan

si alguien se anima tanto el cómic como la película arrugas merecen la pena son obras de gran calidad

nos enseñan aquello a lo que como sociedad no queremos mirar algo así como lo que está ocurriendo en nuestras residencias

cómic no solo nos enfrentamos con los miedos y las soledades que sobrevienen al final de la vida sino que nos enfrentamos

residenciales plegados al capital con condiciones de trabajo precarias con enfermedad con muertes

como hicimos hace unas semanas cuando hablamos de este tema desde elkarrekin podemos izquierda unida queremos dedicarles un momento a las personas que están en las residencias de nuestra comunidad viviendo resistiendo enfermas perdiendo la vida en unos espacios que deberían proveerles de dignidad y cuidados también queremos mandar un mensaje de ánimo a las trabajadoras de las residencias

sus reivindicaciones han sido lógicas y de justicia social demandan algo tan básico y justo como unas condiciones de trabajo dignas y unos cuidados de calidad para las miles

de las residentes a la ansiedad con la que viven esta situación

unidas a ellas las asociaciones y plataformas ciudadanas denunciando e impulsando iniciativas por un cambio en el modelo residencial son las nuevas protagonistas a las que tenemos que escuchar a las que tenemos que tener en cuenta como es el caso de los informes remitidos por el helduak adi o la plataforma sos residencias

lo que estamos viviendo nos ha dejado ver la fragilidad la insuficiencia

lo que trae la precarización de los servicios públicos con los que contamos que han sido incapaces de dar una respuesta más eficaz se ha puesto de manifiesto la falta de recursos humanos y materiales también hemos podido ver las diferencias entre las residencias forales y de gestión pública y las residencias privadas con o sin plazas concertadas

en uno de los principales focos de contagio por eso desde elkarrekin podemos izquierda unida

nuevo sistema público de cuidados un sistema fuerte público comunitario integral integrado que asegure la calidad de los mismos

eta prekarizatuta dauden zerbitzuei uno de los ejes de ese sistema de cuidados el de los centros residenciales se debe configurar en torno a un modelo basado en el concepto hogar y donde la persona sea el núcleo principal de apoyo y de atención debemos abandonar la idea de la plaza residencial en estancias inertes donde transcurre la existencia

un modelo de atención residencial medicalizado debemos repensar y modelar estos centros desde la idea de lugares de crecimiento colectivo y compartido donde seguir desarrollándonos como personas con los cuidados integrales necesarios y hoy quiero destacar y queremos mencionar lo que para

debería incluir desde ya ese modelo residencial lo primero sería hacer una evaluación de la viabilidad de las residencias más afectadas y la incorporación de las mismas a la red pública interviniendo en aquellas en las que la incidencia de positivos sea mayor de un treinta por ciento

sanitario gerontológico proveniente del sistema público que garantice una atención personalizada no solo para

eta ez adinekoen zaintza zentroan jartzeko una adaptación de los protocolos para garantizar la atención y comunicación con las familias de las personas residentes y el acompañamiento en el duelo un sistema que garantice la conversión

antes de la covid ya que la eventualidad en el sector es de un cuarenta por ciento y garantizar la continuidad de las contrataciones del personal que se ha contratado ahora

una inspección laboral fiable asegurando que todas las personas trabajadoras en residencias

y que las ratios de atención no se vean afectadas por una emergencia muy importante para nosotras es la creación de un consejo de participación en todas las residencias donde se impulse la por participación de trabajadoras

hay que evitar que el aislamiento físico sea también social y emocional y extender

a la red de residencias privadas de las que no se sabe con certeza su situación no se debería poder subcontratar a empresas privadas que no tengan convenio laboral el cuidado de los mayores y la salud de las trabajadoras debe ser garantizado kasu honetan esku hartze publikoarekin ere bermatuta dago gure adinekoen zaintza

de paco roca que nació por la necesidad de comprender hace ya más de diez años que ahora tenemos la necesidad de avanzar a día de hoy a pesar de los proyectos y avances en materia de residencias que se han dado en nuestra comunidad mantenemos un modelo que como el espejo de la obra nos devuelve la imagen de que no podemos seguir así

transitar hacia un modelo de cuidados un nuevo modelo de cuidados para los últimos años de la vida y un nuevo modelo residencial donde nos gustaría

serán temas que los grupos entendemos que preocupan a los ciudadanos no son solo temas además que se están presentando

que vienen de iniciativas de la legislatura anterior igual también ustedes tienen que hacer alguna reflexión quizás es porque los mandatos

quizás es porque este gobierno no está a la altura de las circunstancias quizás

compromisos adquiridos en esta materia quiero decir que nada es casualidad y que sean temas recurrentes y temas importantes y además son tenas que preocupan a la ciudadanía y son temas que están en este momento encima de la mesa

llamaban mañana tarde y noche aunque no fueran los proponentes de las iniciativas

hasta bien tarde porque a los grupos que apoyan el gobierno les interesaban porque no estaban en una situación de mayoría si yo entiendo que ustedes

pero entonces no nos digan luego que quieren ensanchar los acuerdos es decir no se hagan ustedes mismos trampas en el solitario es decir si ustedes quieren ensanchar los acuerdos es que se pongan a ello y traten de ensanchar y agrandar esos acuerdos y buscar mayores

pues un mayor consenso en relación a las propuestas que se pueden aprobar en esta cámara

buscar acuerdos más amplios y luego ustedes no hacen nada

alarmista yo creo que se están poniendo las cosas encima de la mesa y encima yo creo que los datos acompañan a la

se trata de poner encima como decía esa realidad que los datos la corroboran desgraciadamente el porcentaje de fallecidos del total de

casi el treinta y siete por ciento ha sido en las residencias por no hablar de todas las personas

por no hablar de que las residencias ha sido uno de los principales focos de contagio por no hablar de las decisiones erróneas también

y trasladarlo a otros centros con lo que supuso eso de perjuicio para las propias personas mayores muchas personas con enfermedades crónicas y para sus propias

de humildad y dejar a veces la autocomplacencia a este gobierno le vendría bien y creo que

que tenemos y la atención a nuestros mayores pero tenemos que ser conscientes de que en este caso pues hay

en las residencias y en la gestión de las residencias en el día a día que estaban ahí que ahora sin duda han aflorado en la gestión de esta pandemia y lo único que se pretende

de la situación que se detecten dónde han estado los fallos los errores
y que se adopten las medidas oportunas nada más con total humildad y con un espíritu absolutamente constructivo besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea eh bildu

dos debates si bien hace dos semanas hablamos específicamente de la gestión de la crisis en los centros residenciales de personas mayores en nuestra comunidad

en torno a la regulación de los centros residenciales aprobada en julio del año pasado publicada en septiembre del año pasado y solicitada la revisión por parte este parlamento en octubre hecha esa diferenciación sí un apunte un apunte porque no tuve

en torno a la gestión de la crisis en los centros yo creo que es importante que ciertos discursos en torno a a veces un poco grandilocuentes en torno a lo que se ha hecho o se ha invertido pues hay que verlos en comparación

de trasladar esa realidad claro si vamos al presupuesto del mes de agosto al gasto social

a agosto del año anterior incrementos de en torno a uno dos tres el más elevado

dicho lo cual vayamos a una cuestión a la cuestión que nos ocupa que es la cuestión del decreto

que sinceráramos las propuestas las propuestas políticas que cada uno cada una defiende entonces sí que quería hacer algunas una pregunta de hecho me voy a limitar a hacer una pregunta bueno se nos está hablando se ha escrito en el programa

la consejera para preguntarle directamente y también ha recordado

que el compromiso es en torno a la revisión creo revisión y adecuación del decreto

revisar y adecuar el decreto ciento veintiséis barra dos mil diecinueve ese es el planteamiento

porque se nos ha dicho y se ha dicho hoy mismo y en debates anteriores que se va a aprender de lo ocurrido no es así se va a aprender de lo ocurrido

se va a modificar si procediera el decreto ciento veintiséis barra dos mil diecinueve es así consejera basta con que me asienta con la cabeza eso es lo que se va a hacer no

sí eso es lo que se va a hacer ah no sabe lo que se va a hacer entonces claro porque esto me genera un poco de sorpresa y me genera un poquito de sorpresa

porque claro cuando se nos dice una y otra vez ahora ahora

ese decreto aprobado en julio del año pasado con el aprendizaje de la gestión de la crisis

algunas dudas porque este decreto no está en vigor este decreto tiene en su disposición adicional

por lo tanto entraría plenamente en vigor en cuanto a requisitos materiales y de personal

durante la crisis por el decreto del año noventa y ocho en cuanto a requisitos materiales funcionales y de personal

entonces claro me sorprende un poco claro dirán

sabemos qué norma se estaba aplicando durante la crisis y bajo qué decretos se han estado rigiendo los centros residenciales de personas mayores

es normal sentir frustración por lo tanto seguro que

y en la oportunidad que tendrá el lunes para explicarnos detalladamente qué pretende hacer con ese decreto que se aprobó

que no ha sido el que ha regido durante la gestión de la crisis que ha seguido

un decreto del año noventa y ocho porque

que no son plenamente vigentes y que tienen dos años para adaptarse

que muchos centros decían que para adaptarse a la realidad del nuevo decreto y está por escrito y lo pueden consultar en el expediente del decreto tenían que despedir a personal

no me utilice un pleno ordinario para hacer preguntas a la consejera de igualdad políticas sociales y justicia la señora artolazabal

y usted intenta que le conteste pues evidentemente utilice un pleno de control o vaya usted a la comisión del próximo lunes donde nos presentará todas las líneas de acción del gobierno

para que le pueda contestar y estoy segura que lo hará y muy ampliamente señora garrido que digan ustedes

que las medidas han llegado tarde que ha faltado liderazgo me sorprende un montón y seguro que a muchos de los de aquí nos deja un poco perplejos porque qué han hecho ustedes en la comunidad de madrid usted viene aquí de bueno

pide a los demás que que pone dudas de todo lo que se hace que faltan test que faltan equipos que faltan criterios pero qué han hecho ustedes en la comunidad

eso no es así si es la comunidad además que más fondos ha recibido para aplicar durante toda la pandemia

ustedes lo que han hecho en madrid no ha sido buscar soluciones no han tenido liderazgo lo que han hecho es buscar el confrontamiento con el gobierno de españa es intentar a través de esa confrontación intentar castigar

de españa no buscar las soluciones y sobre todo desde luego primar lo económico sobre la salud de las personas eso es lo que ustedes nos están demostrando que hacen y que han hecho y que siguen haciendo en la comunidad de madrid y nos dice que no hemos buscado los demás

si usted ha presentado la iniciativa usted tome la iniciativa de intentar llegar a un acuerdo por qué no nos ha llamado a nadie por qué no lo ha intentado porque usted misma sabe

no cree en lo que está presentando y no lo defiende para buscar los acuerdos con el resto de grupos si usted creyera que puede llegar a un acuerdo lo hubiera intentado no le echen la culpa a los demás de lo usted no ha hecho porque usted

y es la que tenía que haber tomado esa iniciativa valga la redundancia por eso nosotros

intervención presentamos una enmienda a la totalidad al ser bastante similares los puntos que se recogían dentro de esta

en el pleno del ocho de octubre y por eso nosotros vamos a defender la misma enmienda a la totalidad porque en la misma también se recoge

las medidas que queremos llevar a cabo y se recoge también que nosotros queremos revisar el modelo integral de atención sociosanitaria

los compromisos de este gobierno en esta materia nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak

y que el objetivo es poner el tema encima de la mesa me parece bien pero es que con poner el tema encima de la mesa pues no se consigue nada o sea hace falta acuerdo hace falta diálogo que es precisamente lo que no hemos tenido doce minutos

doce minutos has tardado en decir la palabra rodillo estaba esperando estaba esperando a ver cuánto tiempo tardabas y es lo que decía la señora sánchez

que si es usted la que trae aquí la iniciativa tendrá que ser usted la que tome la iniciativa de hablar con los grupos y de intentar acordar

pero pero vamos eso de traer a la mesa con traer a la mesa no se solucionan aquí las cosas

por qué esta vez no ha habido esa voluntad de acuerdo yo creo que porque hay un objetivo claro y el objetivo claro no es consensuar

bertatik quería agradecer

es un tema que preocupa por eso es recurrente yo creo que las tres veces que ha salido en estos plenos

se nos haya ocurrido no es porque sean ideas peregrinas no es porque tengamos ganas de estar hablando siempre de las mismas cosas yo imagino que eso nos pasa a todas pero sí que es verdad

en la sociedad que están en la calle que están que nos trasladan a los grupos políticos que nosotras estamos aquí para dar voz a muchos colectivos a muchas plataformas a muchas asociaciones

que nos siente como referente y que nosotras traemos aquí lo que consideramos que tenemos que traer a un debate político

en un mes en plenos quiere decir algo y yo creo que quiere decir algo muy importante no nos podemos olvidar que todo el afán privatizador y economicista

y que esos criterios que solo buscaban la rentabilidad económica han traído

mucha precariedad social y ahora sanitaria bueno por resumir porque tampoco

ni decirle nada a la señora sánchez ni decirle nada a la señora ipiñazar nuestro grupo mi grupo está aquí para llegar a acuerdos nosotras sabemos que lo que subyace de todo esto es que el modelo de cuidados es el que tenemos que pensar y replantear y no igual no parcelar no venir aquí diciendo qué modelo de cuidados respecto al tema de las residencias es que el gordo

y que no nos tenemos que sentar solo nosotras solo los grupos políticos es que

de sentarnos y hablar tenemos que invitar a la sociedad civil organizada porque incluso para el modelo de residencias tenemos que escuchar

como representantes políticas que traigamos estos temas aquí que hablemos de ello

rápida están babestu gipuzkoako senideak

movimiento de pensionistas y tantas y tantas asociaciones que nos están diciendo poneros las pilas

el modelo de cuidados no es solo de residencias aunque en este caso y en este punto estemos hablando de residencias es mucho más y esto es una labor de todas

decía paco roca una de las frases que tiene quédate unos días más aquí

a la deriva sin un sueño y mi grupo parlamentario viene con el sueño de que acabemos hablando de cuidados todas eskerrik asko

gracias presidenta consejeros señorías

yo me sumo también al reconocimiento que ha hecho la señora ubera pues a

en momentos como este además tanta gente vinculada al deporte escolar a tantos

en el deporte escolar y con la actividad física en general de también de otros colectivos no hemos querido dar importancia al deporte escolar porque es un elemento básico tiene que tener una prioridad

la iniciativa es interesante no la presentada por la señora

enmienda de transacción con la que estamos básicamente de acuerdo

en la medida en que podamos dar un pequeño pasos más en la exigencia y en las garantías de la organización del deporte del escolar

de referencia el deporte escolar que es competencia de las diputaciones forales y

la ayuda la cooperación la colaboración del gobierno vasco con esas instituciones con las diputaciones forales que son las competentes o con otras con los ayuntamientos con todas las que pueden hacer algo por el fortalecimiento del deporte escolar

y por el desarrollo del deporte escolar o sea que las competencias están donde están pero

en determinadas cuestiones del deporte en términos generales

del deporte escolar nosotros hemos presentado presentamos una enmienda de impulso del deporte escolar y al conjunto de la actividad deportiva federada y no federada y nos hemos concentrado

joven eso es importante no claro hoy se están jugando las competiciones deportivas

impacta en los niños en los jóvenes y desarrolla también su capacidad y su necesidad de compartir una actividad

que les forma que les socializa y que les protege no por eso es tan importante el deporte hay que tenerlo como un elemento básico y el deporte escolar de una manera esencial no a mí me parece bien en ese sentido pues la enmienda de transacción recoge también

cuestiones que hemos planteado que planteamos el día veintiocho de septiembre está claro que

de la situación sanitaria pero bueno pero en cualquier caso tenemos que poner la prioridad y el acento en el impulso al deporte escolar ahora

se deben superar ese es el elemento fundamental hay que hacer deporte y hay que apoyar esencialmente el deporte escolar el deporte escolar es fundamental en el proceso formativo de niños y niñas de jóvenes y debe ser objeto de atención

integral en el proceso formativo y como hemos dicho y como se ha dicho en el proceso

la mejor política preventiva de enfermedades es el ejercicio físico es el deporte sin ir más lejos el otro día un entrenador de deporte escolar con el que hablaba me comentaba que los niños y las niñas o los niños él sobre todo trabaja con niños que habían llegado

con mucho sobrepeso la mayoría de ellos y algunos con una sensación de cansancio o un poco

les vio quizá menos vitales que en el proceso de conocerles que estando entrenando estando y la competición que también es básica y que es fundamental en esas edades en relación con la

que organizan ellos el deporte escolar o sea que yo creo que al final hay motivos pues para seguir pensando que hay que trabajar duro

son competentes en el deporte escolar y desde luego pues hay que apoyarles y el gobierno vasco lo tiene que hacer nosotros habíamos planteado cuatro puntos

efectivamente la declaración de este parlamento que ya lo ha hecho en la enmienda de transacción de que el deporte escolar debe ser objeto de atención preferente por parte de las instituciones forales y educativas lo es ya sabemos pero debe serlo y además pedíamos esa colaboración del gobierno vasco en la puesta en marcha

responsabilidades o sea lógicamente el hacer eso un concierto importante en relación con el apoyo al deporte escolar hablábamos de colaborar con las diputaciones forales en la recuperación de las competiciones

y el deporte escolar dentro de su organización mucho más importante muy importante importantísimo

por muchas referencias que tienen los jóvenes y los niños en esa competición fortalece capacidades fortalece además

a otros ámbitos sociales a las federaciones deportivas a los clubes

va aprendido mucho más cómo socializar y cómo adquirir valores relevantes

la actividad física de mantenimiento como la competición

decíamos que bueno que colaborase para las mejores condiciones de la práctica deportiva o de las instalaciones hoy sabemos que puede haber sitios

pues no perfectamente adecuados o con complicaciones estructurales o físicas

ayudar a las instituciones o a los clubes o a las instalaciones a los ayuntamientos

deportivas y también hablábamos finalmente y tenemos una iniciativa que presentaremos próximamente sobre el consejo vasco del deporte

que dependen de este gobierno que no se reúnen que no funcionan que no dictaminan

son extraordinarios porque cómo define las funciones no el consejo vasco del deporte tiene un montón de funciones importantes todas de propuesta de información de asesoramiento de sugerencias de memorias anuales y

y hay momentos esenciales en el que además están compuestos por gente muy importante de las federaciones de los deportes de las diputaciones de los ayuntamientos del gobierno de los clubes es necesario que órganos como este se reúnan y en estos momentos analicen juntamente con las instituciones las necesidades que tenemos eso es importante que se desarrolle y que se ponga en marcha

que da pena verlo porque es que no se ha reunido casi nada y

vamos absolutamente insuficiente para el alto propósito con el que se creó que no solamente era una foto de constitución o de inauguración sino que era mucho más no hay más que leer el decreto de su constitución vuelvo a decir estoy de acuerdo con la enmienda básicamente me

muy importante y que hay que tiene que ser prioritario el hecho de que se pueda adoptar

en cualquier caso pues bueno si es un paso más pues lo apoyamos muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

la iniciativa que hoy traemos aquí está enmarcada en el departamento de política lingüística y cultura pero también podría situarse en el departamento de salud por la importancia que tiene el deporte en la salud de las personas el deporte hoy en día es mucho más que una mera actividad física

la cual podemos mejorar nuestra salud nuestra forma de vivir mejor

es una tarea complicada tenemos que recordar y valorar que en estos días de confinamiento hemos visto cómo el deporte

y nos ha ayudado a mantener nuestro cuerpo activo con lo que eso tiene de importante para nuestra salud y no en vano una de las primeras actividades que se permitieron hacer al iniciar la desescalada

salir a pasear y a hacer ejercicio físico desde elkarrekin podemos pensamos que la educación física y el deporte escolar no pueden caer en el olvido

ha de ser apoyada con toda garantía hablar de deporte no es solo hablar de juego y competición también es hablar

que tiene lugar dentro y fuera del terreno deportivo si por exceso de celo alejamos todavía más a las niñas y a los niños de la educación física

causa esta por otro lado muy preocupante pero junto a esta faceta de deporte individual deporte colectivo deporte en grupo

el deporte escolar o los juegos escolares todo esto se quedó paralizado

el tejido deportivo se ha quedado muy dañado el número de inscripciones que se están formalizando ahora mismo con el deporte con el inicio del deporte es un cuarenta por ciento menor que las del año pasado y esto no solo conlleva un perjuicio social sino también lleva perjuicios de salud laboral de salud y laboral perdón

hay que tener en cuenta que mantener y elevar la participación sobre todo

tasas elevadas en las siguientes categorías y lo que es mejor

el grupo elkarrekin podemos izquierda unida al grupo elkarrekin podemos izquierda unida nos parece

las medidas necesarias que sean necesarias para participar para

no se vea en más dificultades de las que ya tiene y con todo y todo ello con el objetivo de que el derecho al deporte sea una realidad

internacional de la educación física y el deporte el derecho del deporte no solo debe verse desde la dimensión del deporte del alto rendimiento sino que trae consigo la promoción de todas las prácticas deportivas para todos los niveles desde los niños y las niñas que tienen contacto con en la primera infancia pasando por todos los niveles educativos asimismo

a las personas mayores a las personas diversas lo cual implica no solo garantizar su acceso en las mismas condiciones sino promover el deporte para quienes se encuentran para quienes se encuentran en una situación de desigual por ello se han de ofrecer posibilidades inclusivas adaptadas y seguras para

como he comentado al inicio de mi intervención el deporte es mucho más que la mera práctica de actividad física es una potente herramienta para las relaciones interpersonales para mejorar nuestra salud

en su relación con el deporte así como en otros ámbitos de nuestra vida las mujeres han conseguido entrar con mucha fuerza en el deporte todavía no ha permeado en toda la sociedad son muchos los aspectos en los que se ve esta desigualdad presidentas de federación

son las menos son muchos a día de hoy los que ven con cierta crítica que niñas y mujeres participen en ciertos deportes sea en su variante más relacionada con el ocio o en su variante de competición deportiva

se adscriben ciertos deportes aún quedan muchas barreras culturales que romper y creemos que no es redundante volver a traer aquí este tema

también es igualdad la participación de las mujeres en el deporte de elite va mejorando

que dicha participación ha de replicarse también en el deporte base

fomentar y promover el acceso y la participación de las mujeres en el ámbito deportivo

la visibilización en la gestión en la práctica y en cualquier actividad deportiva no hay que menospreciar el papel que juega el deporte en la discriminación la invisibilización de la mujer en los más media

o carencia de referentes sea un factor muy importante en la continuidad o el abandono de la práctica deportiva de hecho esta urgencia la de incorporar la perspectiva de

el reconocimiento la visibilización y la potenciación del deporte femenino es una herramienta clave para romper estereotipos y reimaginar sociedades más igualitarias sin roles predeterminados con la libertad de que cada uno sea lo que quiera ser somos conscientes

estrategia planes y áreas de igualdad en el ámbito del deporte lo que nos preguntamos es qué ha mejorado desde el año dos mil cuatro porque en los análisis de los informes posteriores dos mil trece quince y dieciséis se siguen se siguen replicando las

la existencia de estereotipos y el abandono por parte de las chicas al inicio de su edad juvenil con ello

dar un impulso a las políticas feministas que se tienen en el deporte

y nos preguntamos qué soluciones concretas está manejando el gobierno vasco para

muchas gracias por todo eskerrik asko angulo jauna

los socialistas vascos estamos muy comprometidos con el fomento de la actividad física y el deporte

se demuestra allá donde tenemos la oportunidad de gestionar esta materia como puede ser en este caso la diputación foral de gipuzkoa y lo hacemos porque creemos que son dos elementos claves en el desarrollo y en el bienestar de la ciudadanía

a la salud física y mental y a la mejora de la calidad de vida de la población somos conscientes evidentemente de que el deporte es el cauce esa es nuestra idea para avanzar hacia una sociedad más equitativa más justa y más cohesionada especialmente cuando hablamos

se trata de un elemento clave que permite y mejora su desarrollo emocional y social por ello a pesar de las actuales circunstancias en relación con la covid nuestro grupo ha impulsado y se ha mostrado siempre favorable a las medidas que permitan a toda la ciudadanía tener acceso a la actividad física y el deporte y es importante ese matiz de a toda la ciudadanía y que paralizar la actividad física

sin lugar a dudas y en esta situación más graves prejuicios sobre todo

para la población más vulnerable en general se resiente

de la falta de actividad física en una situación como la que tenemos en este momento no obstante el acceso al deporte en la vuelta a eso que se llama nueva normalidad y que cada vez por desgracia es más anormal esto se debe hacer bajo unos estándares mínimos que traten al menos de garantizar la seguridad de los participantes y en el caso de los espectáculos deportivos del público

y por supuesto del gobierno vasco no podemos olvidar hace apenas un mes tuvo la incorporación de miles y miles de alumnos de infantil preescolar educación primaria a los centros escolares vascos suponiendo un factor a tener en cuenta en el desarrollo de las medidas de seguridad

para ello ha sido necesario observar los resultados sobre las incidencias relacionadas con la covid hemos hablado ya de este tema al menos en dos ocasiones en este parlamento

este análisis hemos podido observar que afortunadamente la incidencia ha sido minoritaria en el caso de los rebrotes en las aulas y de la propagación

en el ámbito escolar no lo décimos los socialistas lo dicen los estudios de los epidemiólogos después de que se ha producido la incorporación a las aulas en el comienzo del curso escolar tras el análisis de las condiciones epidemiológicas relacionadas con la vuelta al colegio

ha sido permitir el desarrollo gradual y progresivo de las actividades deportivas escolares con un objetivo prioritario garantizar la salud de las personas implicadas como he mencionado anteriormente a pesar de ser conscientes de que aquí como en todos los órdenes de la vida en este momento el riesgo cero no existe

guipúzcoa y álava contando con el apoyo del gobierno vasco

y entidades deportivas para permitir que los niños y niñas de los tres territorios puedan volver a realizar este tipo de actividades de forma segura y de forma eficaz de esa manera como se están haciendo eco en los medios de comunicación esta semana está teniendo lugar el retorno

de manera paulatina y permitiendo entrenamientos en grupos burbuja a esperas de evaluar la posible vuelta también de las competiciones en cuanto sea posible

la promoción del deporte nos parece un elemento esencial en cualquier sociedad que conlleva beneficios

de estos y digo más la promoción del deporte a toda la población

nivelador si no establecemos una política de extensión de la actividad física y el deporte a todas las capas sociales especialmente a las más vulnerables

y no es eso lo que nosotros pretendemos con este objetivo queremos destacar el esfuerzo llevado a cabo por las diputaciones en colaboración con el gobierno para poder llevar a cabo el programa mugiment al que hacía referencia la señora ubera

junto a los ayuntamientos y otras organizaciones en la búsqueda de impulsar nuevos hábitos deportivos en los ciudadanos ese programa lo forman ochenta y seis entidades

el objetivo de impulsar el deporte en la lucha contra el sedentarismo más importante que nunca en un periodo en el que ha habido confinamientos y es posible que pueda volver a haberlos

cuyos hábitos debían verse modificados personas con sobrepeso ciudadanos de mayor edad con enfermedades cardiovasculares

y orientadores encargados de la identificación de los pacientes y de la realización de las rutinas deportivas evidentemente no todo es perfecto no todo se está desarrollando a plena satisfacción

mejorando los protocolos y la extensión generalizada del deporte no todo es seguidismo de lo que se hace en madrid se trata de mejorar el servicio y sobre todo de hacerlo coordinadamente por último nos parece importante mencionar la orden publicada el diecinueve de agosto del dos mil veinte de la consejería de salud en la que se sientan las bases para el retorno de las actividades deportivas tras la primera ola de la pandemia

la educación física y la salud tienen mucho que ver especialmente en estos momentos pues bien esta norma establece los criterios sanitarios mínimos

que pueden ser adaptados mediante protocolos de actuación por las entidades deportivas y ayuntamientos para intentar evitar y reducir al mínimo el riesgo de nuevos brotes creo que en esta oración y aunque ha sido en el último minuto hemos conseguido hacer una enmienda

barrio y que trata de recoger todas esas aspiraciones y criterios que tenía cada uno el que se considere una actitud una actividad preferente

lógicamente a la evolución de la pandemia y proponga alternativas hacia los grupos prioritarios también se insta

de la actuación de la dirección de actividad física y deporte y lo lleve también a ese famoso consejo vasco de deporte que como nos anunciaba el señor barrio tendremos ocasión de debatir sobre él en próximas fechas e insta al gobierno vasco a seguir profundizando en la promoción e incorporación

de género en la actividad física y deportiva en cualquier caso creo que podemos felicitarnos porque es un buen acuerdo un primer paso

como la que tenemos tratar de alcanzar siempre en temas troncales para la sociedad el máximo acuerdo posible de la forma

e inteligencia como creo que hemos sido todos capaces de hacer para dar la luz
a este documento que vamos a pasar posteriormente a votación eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak molina andrea zurea da hitza

la promoción y el impulso de la práctica deportiva han estado están y seguirán estando en la agenda de las instituciones el programa de gobierno lo recoge en su compromiso ciento veintiuno

y situar a euskadi entre las sociedades más activas de europa

a todo euskadi para promover la práctica deportiva de todos los vascos y las vascas a través del uso de las instalaciones públicas deportivas y por otro potenciar los programas que fomentan la práctica deportiva como mugiment que aquí se ha comentado y que efectivamente se trata de un proyecto estratégico

interinstitucional y que según usted señora ubera no funciona bien aunque a mí me gustaría saber para usted qué es lo que realmente funciona bien y lo cierto es que tan mal no funcionará cuando ha recibido el premio estrategia naos

física en el ámbito familiar y comunitario del ministerio de consumo

como elemento de igualdad integración y fomento del euskera a estas alturas todas y todos somos conscientes de que el coronavirus afecta a cada ámbito de nuestra vida y de nuestra sociedad y la práctica deportiva la actividad física y el deporte tampoco

el virus sigue ahí y convivir con él no es tarea fácil pero entre todos y todas tenemos que garantizar que las actividades que se desarrollen

afortunadamente este gobierno ha trabajado desde el primer minuto en esa dirección y ha tomado medidas para ofrecer las máximas garantías de seguridad

o necesidades que tuviese la ciudadanía sobre la vuelta a la actividad física cinco técnicos responden exclusivamente todas las cuestiones

en agosto el gobierno vasco las tres diputaciones forales y las federaciones cerraron las normas generales de actuación ante el covid diecinueve para el actual curso de deporte escolar y no solo eso en junio el departamento publicó las recomendaciones generales de salud pública para la elaboración de planes específicos sectoriales dirigidos a minimizar y controlar

las consideraciones para la eventual celebración de competiciones deportivas

la guía para el inicio de entrenamientos protocolo funcionamientos de clubes medidas preventivas la guía de recomendaciones para una nueva normalidad en el ámbito de la actividad física y el deporte incluso

deportiva y además de todas esas normas y recomendaciones el departamento ha desarrollado cuarenta normas específicas para cuarenta modalidades deportivas y todo ello

en todas ellas se especifica además que se deberán adaptar a la situación sanitaria en cada momento puesto que la situación de la pandemia es cambiante y eso nos obliga obviamente a actuar siempre con la máxima prudencia

el deporte vasco fue el primero en volver a los entrenamientos profesionales lo hizo con la pelota el remo y los herri kirolak gracias a la coordinación institucional

todo esto demuestra que el departamento y el gobierno vasco trabajan constantemente y de forma coordinada con el resto de instituciones y agentes

en la práctica deportiva desde nuestro grupo entendemos la incertidumbre de las familias y las dudas ante cuándo se retomará la vuelta al deporte escolar incluso ante cuándo

pero la situación epidemiológica actual no permite que estas actividades se desarrollen con normalidad especialmente las competiciones señor barrio y en ese sentido las instituciones siempre han trabajado con la intención de que haya deporte escolar para no dejar a nadie atrás señora ubera para asegurar una alternativa a las familias que no disponen de medios o recursos

en todo momento han tratado de ofrecer esas garantías a las familias y al alumnado y de hecho las diputaciones han ampliado el plazo de inscripción de niños y niñas en el deporte escolar hasta diciembre incluso manteniendo los entrenamientos para garantizar ese acceso a la actividad física pero obviamente

de la pandemia en cada momento y miren si las instituciones están trabajando desde el primer momento para retornar al deporte escolar que a día de hoy

que se requiere de prevención y seguridad ante el covid pero es que no todo depende exclusivamente del departamento ni de las diputaciones

la organización de esas actividades dependerá de la elección de los centros educativos o clubes y desde nuestro grupo por supuesto que también reconocemos el enorme esfuerzo que están haciendo para adaptarse bueno creo que todos los grupos coincidimos

vida saludable y esos valores que tiene para la sociedad y por eso hemos llegado a un acuerdo de transacción

extenderme mucho puesto que ya lo ha hecho el señor pastor pero sí que considerábamos interesante llegar entre todos bueno al final

con el apoyo del señor barrio que le parecía interesante pero no ha querido

negociación le animo a que lo haga en la próxima seguro que en la del consejo vasco tiene un poquito más

nosotros consideramos que las prisas no son buenas y que la mejor aliada de esta pandemia es la prudencia porque nos lleva aunque nos lleve más tiempo volver a la normalidad hay que hacerlo con seguridad y qué más quisiéramos

desgraciadamente los criterios y la adopción de medidas están condicionadas por la pandemia nadie puede ofrecer certezas en estos momentos pero el gobierno vasco sí que ofrece medidas de responsabilidad y sentido común para proteger a la ciudadanía y evitar la propagación del virus mientras tratamos de llevar una vida acorde con la nueva normalidad o al menos que se parezca lo más posible a la antigua normalidad y creemos que es un acuerdo un buen acuerdo porque nosotros y nosotras

partido socialista considerábamos realista que la medida

sobre todo principalmente de tener en cuenta la situación epidemiológica de cada momento y eso es lo que hemos tratado de reflejar en ese acuerdo

señora molina en vez de dedicarnos tanto a ponernos las medallas

a ver qué estamos haciendo bien y cómo podemos mejorar no porque yo creo que todos tenemos mucho por mejorar

para nosotros en esta iniciativa y en la situación que estamos viviendo la expectativa de la competición deportiva es muy importante

deportivas que se mueven en el deporte escolar sin ir más lejos en relación con esa cuestión es decir la sociedad se ha movido mucho y muy rápido en relación con

en la mente del deportista y en la mente del deportista joven mucho más está la competición es decir

antes con un valor formativo con un valor de socializador educativo es decir

se han superado limitaciones en relación con otro tipo de competición

o escolar también la competición sigue siendo importante por eso nosotros

en la transacción no hablar de hablar de dar los pasos hablar de seguir haciendo el esfuerzo por recuperar la competición la entendemos básica pero en cualquier caso pues votaremos a favor porque un pequeño pasito es

en el que estemos todas incluidas gracias eskerrik asko

se toman por necesidad no por gusto eh y no van contra los colectivos ni contra las familias ni contra la ciudadanía van en favor de la ciudadanía precisamente y aquí

cuando se habla de tomar esas medidas no sé pues tendríamos que preguntarle por ejemplo a su portavoz

para trasladarle que haya medidas más contundentes pues habría que preguntarle cómo van a afectar esas medidas contundentes al deporte escolar tiene la solución yo

por la salud y la seguridad de todos y de todas porque dicen menos medallas menos medallas

a esa persona que está desde su casa en el sofá cómodamente con sus patatas fritas viendo un partido de fútbol o de lo que sea sí y criticando a los que de verdad están dando el callo ahí pero ustedes desde la postura cómoda muy cómoda cuando quieran colaborar pues aquí estaremos porque cualquiera diría además que no hemos llegado a un acuerdo dado

y luego también claro quieren volver ustedes al deporte escolar ya y como si nada pasase pero no decían ustedes que los centros escolares no eran lugares seguros

porque el deporte sí que se desarrolla allí o sea comedores aulas no pero deporte sí muy bien pues sigan ustedes con su actitud de incoherencia y luego sí que me gustaría resaltar también para que cuando hablen ustedes con esa ligereza del rodillo bueno pues se acuerden un poquito un poquito ya vale por su parte del rodillo porque

o sea que a ver si se acuerda de este acuerdo valga la redundancia cuando se tenga intención de mencionar el rodillo eskerrik asko molina andrea

cuestiones pero decía la señora consejera que además es la misma consejera que la legislatura pasada la señora artolazabal en su comparecencia a principios de la legislatura como decía la última legislatura

que los principales retos del departamento de empleo y políticas sociales eran por un lado la reforma de lanbide y la reforma del sistema

la modificación de la ley para la garantía de ingresos y la inclusión social pues transcurridos cuatro años de la legislatura anterior

los compromisos adquiridos en esta materia no se han cumplido es decir

en esta materia concreta en relación a la reforma de lanbide la reforma del sistema de

es negativo berriro alderdi popularra

y que las deficiencias persisten persisten porque obviamente no se han adoptado las medidas no se han impulsado aquellas iniciativas que eran necesarias para paliar

en estas materias en estos asuntos esta parlamentaria que

como todos ustedes saben especialmente algunos parlamentarios que han tenido que escucharme en esta

temas ha formulado varias interpelaciones también a la señora consejera en relación a los motivos que estaban llevando a retrasar

al principio de la legislatura y los motivos también que llevaba a este gobierno a no cumplir con los compromisos adquiridos en relación a estas cuestiones que hoy traemos a esta cámara claramente décimos que este gobierno ha incumplido sus compromisos en las dos materias en relación a la remisión de un proyecto de ley

inclusión social estaba previsto la remisión de este proyecto de ley

en forma de proyecto una modificación legislativa en este caso de una ley vigente de una ley en vigor a través de un proyecto de ley que tenía que remitirse o aprobarse mejor dicho en consejo de gobierno y posteriormente remitirse a esta cámara antes del segundo cuatrimestre de dos mil dieciocho como el gobierno no hizo los deberes como todos sabemos

desarrollando su propia iniciativa una proposición de ley de modificación de esta ley nosotros denunciamos en ese momento las formas

de los debidos informes preceptivos pensábamos también que obviamente

este gobierno cuando ya la consejera desgranó en marzo del dos mil diecisiete las líneas generales que luego se recogieron en esta proposición de ley

dicho proyecto de ley si tenemos en cuenta el plazo que siempre nos ha dicho el señor erkoreka

en tiempo y en forma y no fue así y por lo tanto pues

con el objeto de abrir el debate posibilitamos la tramitación de la proposición de ley presentada por el partido nacionalista y el partido socialista

también tenemos que decir que las múltiples deficiencias también están ahí nosotros y nuestro objetivo es que se convierta en un verdadero servicio

para cumplir el objetivo de la empleabilidad creemos que el sistema de protección tiene que tener puerta de entrada y puerta de salida es cierto que las circunstancias actuales son muy complicadas y habrá que reforzar el sistema de protección y obviamente ese es un reto señora consejera que usted también

y sobre todo que las ayudas y en un escenario tan complicado como el que tenemos las ayudas lleguen a las personas que realmente lo necesitan pero volviendo a lanbide lanbide tiene que revisar sus funciones tiene que adoptar medidas para cumplir los objetivos que tiene encomendados y sobre todo en tres funciones concretas como son la orientación la formación y la intermediación

en la orientación en la formación diseñando itinerarios formativos absolutamente individualizados pero haciendo un seguimiento de esos itinerarios no puede ser que a una persona que va a lanbide

de aquella forma y no se haga un seguimiento de esos planes

a nuestro juicio no son ahora en absoluto personalizados y adaptados a las circunstancias de empleabilidad

persona que se dirige a lanbide la intermediación también aquí se ha fallado en este asunto en relación a la intermediación

lanbide sea un servicio de referencia para los ciudadanos vascos ya nos decía el viceconsejero

que su hijo le decía que si tiene que buscar un empleo que lo último que se le ocurra es ir a las páginas de lanbide eso no puede ser así lanbide se tiene que convertir en un servicio de referencia no solo para los ciudadanos sino para las empresas vascas

que he traído que este grupo la pasada legislatura el partido popular pero esta legislatura partido popular y ciudadanos que vuelven a traer

para su debate en la que instamos al gobierno vasco a modificar la normativa vigente en relación a las ayudas sociales con la presentación

de modificación de la ley para la garantía de ingresos y la inclusión social

de protección social y un plan ya un plan riguroso serio

los fallos que ha tenido lanbide y que tiene lanbide de hecho

necesarias en un plan de reforma de lanbide con actuaciones concretas

del grupo mixto vox plantea que se presente en el plazo de tres meses un informe pormenorizado de las deficiencias observadas en la tramitación de la rgi haciendo especial hincapié en aquellas que han posibilitado un de las ayudas económicas a nosotros nos parece bien que se analice esta cuestión no nos parece bien ahora

esto ha sido objeto de reivindicación por parte del partido popular

en esta cámara pero sí que es cierto que nosotros consideramos que

soluciones ya sabemos dónde están se producen las situaciones de fraude donde se producen las situaciones irregulares no vamos

me parecía oportuno hacerle esta apreciación que es el momento

soluciones porque el diagnóstico ya está más que realizado después de tantos años de andadura de una ley desde el dos mil ocho con una modificación en el dos mil once como usted

de elkarrekin podemos pues en algunas cosas podemos coincidir pero en otras creo que el planteamiento

sí que apostamos obviamente por tener un servicio un sistema de ayudas sociales que contemple y que sirva para proteger a las personas que están en situación de vulnerabilidad pero creemos que también este sistema presenta fallos y que en estos momentos también hay cuestiones

y que no se produzcan abusos y situaciones abusivas que también entendemos que a día de hoy se producen y que hay que corregirlas y que hay que adoptar medidas para ello para que precisamente estén en el sistema dentro de él las personas que realmente lo necesitan

seguir con lo que se está haciendo y adoptando una posición crítica pues obviamente

que pasemos directamente a apoyar su enmienda a la totalidad sí que como

espero que esta vez sí el gobierno considere estas cuestiones prioritarias en su agenda política y remita un proyecto de ley pues obviamente tendremos oportunidad de hablar creo que sería bueno

sus números y a la aritmética de que suman entre los parlamentarios del partido nacionalista vasco y el partido socialista y que en esa idea de ensanchar acuerdos pues cuando se adopten o se remitan iniciativas a la cámara o se presenten planes

temas pues bueno se pueda tener la oportunidad de contactar con los grupos para que podamos hacer también aportaciones y enriquecer esos textos o también plantear las modificaciones que estimemos oportunas en relación a las

en este parlamento y que por ello no participaba en el debate espero que lo recuerde ya que solamente ha pasado una semana y que tengan la decencia de ser coherentes y seguir la estela no interviniendo en uno de los temas más tratados en este parlamento la rgi les diremos que son más desde

el gobierno a través de lanbide ha sido capaz de colocar este dinero en muchas ocasiones en manos de personas humildes que realmente lo necesitaban

un gobierno razonable tendría como principal preocupación desarrollar líneas de actuación que trasladaran a los ciudadanos perceptores de estas ayudas al mercado laboral y en este campo creo que se ha fracasado combatir la pobreza es un objetivo prioritario para vox consideramos que la manera más justa de hacerlo no es condenar al ciudadano a vivir de la renta pública sino garantizar e incentivar el ejercicio del derecho y deber a trabajar

en situaciones excepcionales de depresión económica como la actual vox no está en contra de que los vascos más necesitados perciban una renta y una ayuda de subsistencia para poder cubrir las necesidades más básicas pero esta medida debe cumplir una serie de condiciones

y extraordinario vinculado a la búsqueda de trabajo con un salario digno que es la forma en que realmente se puede salir de la situación de necesidad sin depender del estado perpetuamente no es viable una ayuda perpetuada en el tiempo que acomoda a la persona a esta situación como dice un refrán

hay que garantizar también la igualdad entre españoles unificando los criterios de acceso en todo el territorio nacional en ningún caso debe suponer un efecto llamada para la inmigración ilegal que puede beneficiarse de ayudas mediante excepciones o lagunas legales

una renta de estas características debe combinarse con una agresiva reducción del gasto político que sea ineficaz de manera que se pueda implementar sin disparar la deuda que pagamos todos los ciudadanos es por ello que solicitamos en nuestra enmienda que en un plazo razonable se elabore el informe que comentaba la portavoz laura garrido

y haciendo especial hincapié en aquellas que han supuesto un uso fraudulento de esta ayuda económica creemos que lanbide puede utilizar todos los avances digitales y de control

y que emplee estos recursos en un control exhaustivo de a quién van destinadas estas ayudas para evitar fraudes y también trabajar activamente para fomentar en el menor

la incorporación de los perceptores al mercado laboral muchas gracias eskerrik asko martínez andrea elkarrekin podemos

eskerrik asko mahaiburu andrea las deficiencias relacionadas

suponen menos del uno por ciento en relación a la renta de garantía de ingresos señora

a usted para retomar ese discurso que tal vez hoy

transmitiendo el partido popular durante muchos años desde el año dos mil catorce en relación a la renta de garantía de ingresos de criminalizar

de una renta como esta y a las personas a las que se debe dirigir la legislación sobre inserción a la legislación sobre la renta de garantía de ingresos

y nosotros lo lamentamos nosotros no vamos a aprobar la iniciativa que trae hoy usted señora garrido

fundamentalmente porque nos parece que viene a reivindicar que se ponga sobre la mesa pues una iniciativa una propuesta que usted ha descrito que finalmente vino en forma de

socialistas vascos que nosotros ya explicamos aquí mi compañera tinixara además de una manera

con mucho conocimiento de causa una iniciativa que no compartíamos porque pensamos que en los términos en los que está planteada en estos momentos es un paso atrás y no un paso adelante yo no voy a hacer el recorrido ya lo ha hecho usted señora garrido el recorrido que tenemos en este parlamento

y yo me alegro de que no haya llegado usted a un acuerdo con

no sé si eso será una señal de algo yo espero ojalá que sí de cambios el otro día escuchamos a la señora mendia en la comisión nosotros esperamos cambios señora garrido nosotros con su iniciativa que es muy genérica

es tan genérico que incluso podríamos estar de acuerdo porque

pues también venimos diciendo desde hace tiempo que son necesarios porque lanbide ha venido funcionando mal desde el principio y que además a raíz de asumir

la renta de garantía la gestión de la renta de garantía de ingresos pues eso ha supuesto una carga de trabajo y unos problemas

que todas y todos conocemos pero usted lo que trae básicamente es que se vuelva a poner sobre la mesa una propuesta

nosotras y nosotros no compartimos porque ya lo dijimos aquí pensamos que es una propuesta que abandona a las mujeres pensamos que es una propuesta

los gastos básicos de una persona en euskadi se pueden cubrir con cuatrocientos cincuenta y cinco euros a la que se le suma una serie de complementos

cuánto pueden cobrar las personas receptoras complementos que se pueden

además y que no se nos explica exactamente por qué y cómo se pueden descontar un sistema que propone un cambio en cuanto a la percepción de la renta para personas jóvenes y que podría parecer

la mayoría de los agentes que venimos reivindicando de bajar a dieciocho años pero que en realidad no la reduce porque pone un requisito de cotización a la seguridad social previo que es muy difícil de cumplir a determinadas edades una propuesta que en estos momentos tal y como está

solo se podrá cobrar una rgi por casa nosotros ya dijimos aquí también

que perdieron la renta de garantía de ingresos miles de personas

a cuatro años y nosotros pensamos que tal y como está ahora mismo la propuesta

porque es un paso atrás y por lo tanto nosotros no vamos a respaldar

y no podemos respaldar la enmienda también que plantean nacionalistas vascos y socialistas vascos especialmente por su punto tercero porque

en esa idea o en esa propuesta que es la que estaba encima de la mesa

de la anterior legislatura y que nosotros no compartimos no compartimos sinceramente y pensamos seguimos pensando que es un paso atrás y nos preocupa y hoy lo hemos visto

de manera suave en la intervención de la señora garrido de manera más potente en el de la portavoz de vox

obsesión con el control con el fraude para este tipo de ayudas pueda tener en la futura reforma que vaya a llevar a cabo este parlamento en una cuestión tan sensible

que se criminalice a las personas más vulnerables que se ponga el foco en el control de ayudas a las personas más vulnerables ya nos gustaría

los fraudes en las altas esferas y creo que de eso el partido de la señora garrido que es la que nos trae hoy la propuesta

este debate pero la propuesta tal y como está en estos momentos desde luego es un paso atrás en ese sentido

que ya lo dijimos también aquí de ciento siete artículos que tiene además setenta remisiones a desarrollo reglamentario una propuesta

dedica veinticinco artículos a ser explicada y en los que hay al menos veintiséis remisiones

una ley por lo tanto que en los términos en los que ahora mismo estaría planteada

poner requisitos nuevos causas de extinción cuantías criterios de sanción y nosotros no estamos de acuerdo con esto pensamos cheque en blanco para que luego se haga y deshaga por lo tanto nosotros no vamos a apoyar su iniciativa señora garrido y hemos propuesto sí hemos registrado una enmienda a la totalidad

de alguna manera ponemos alguna de las cuestiones fundamentales que no solo hemos defendido nosotros sino que hemos escuchado defender a muchos de los agentes que tienen algo que decir sobre esta cuestión

algunas de estas cosas nosotros pensamos que es necesario y así se lo vamos a pedir al partido nacionalista vasco y al partido socialista de euskadi de manera específica

consejera de empleo y trabajo le vamos a pedir un cambio en lo que ahora mismo hay encima de la mesa en relación

renta de garantía de ingresos y también en relación a lanbide pero hoy me quería centrar en el tema de garantía de ingresos porque me parece que viniendo la iniciativa del grupo popular con la matraconería que nos dieron durante años sobre qué era lo que realmente les preocupaba de esta cuestión pues nos parece

por lo que realmente a ellos les obsesiona y ahora con ellos a vox y lo hemos escuchado perfectamente en el discurso de la portavoz de vox ese no es el camino lo que hay ahora encima de la mesa es un paso atrás

a defender de esta manera y por lo tanto vamos a defender nuestra enmienda vamos a rechazar lo que hoy el partido popular ha presentado en esta cámara

muchas gracias presidenta hoy vamos a debatir sobre la reforma de la renta de garantía de ingresos y de lanbide servicio vasco

hemos debatido en la anterior legislatura mucho sobre la necesidad de mejorar el sistema de garantía de ingresos aunque contemos con un buen sistema que nos ha permitido paliar las dificultades mejor que en otras comunidades autónomas pero eso no nos impide mejorar así como también hemos debatido de la necesidad de llevar a cabo una reforma en lanbide pero en estos momentos aún es más necesaria

vicelehendakari y consejera de trabajo y empleo en la comisión de

la señora idoia mendia y en la misma nos indicaba la vicelehendakari que para lograr la máxima eficacia en la recuperación del empleo

hay que lograr la máxima eficacia en la recuperación del empleo y no dejar a nadie atrás y a este departamento le corresponde liderar

y efectivo que conecte las necesidades de las empresas con las necesidades formativas de los trabajadores

la red de protección social aunque sea el mejor sistema que hay a día de hoy en españa para que nadie que lo necesite se quede sin un recurso pero sobre todo para que cada vez haya menos gente que lo necesite porque se consiga una oportunidad para el empleo y puso de manifiesto de una forma extensa que el departamento de trabajo y empleo es clave para abordar la reforma de la ley de garantía de ingresos e inclusión y para la aprobación de una nueva ley del sistema vasco de empleo

por su exposición inicial

enterado todavía que la reforma de la renta de garantía de ingresos ha cambiado de departamento y ahora le va a corresponder al departamento trabajo y empleo los socialistas vascos consideramos que después de lo expuesto en esa comparecencia la iniciativa del grupo

no tenía mucho sentido porque es que no hace falta que venga esa iniciativa presentada por el grupo popular porque ese compromiso ya está recogido y asumido por parte del grupo socialista y por parte del grupo

de gobierno pero en segundo lugar también se puso de manifiesto aquí ante nosotros en la comisión de trabajo y empleo por parte de la

el pasado catorce de octubre por eso lo que voy a entrar ahora a explicar son esos compromisos que la señora

en esa comisión y que son muy extensos y que eso es lo que ha llevado a que nosotros tampoco consideremos que fuera necesario llegar a un acuerdo ni a una enmienda transaccional dentro

se lo he dicho en el punto cuarto pero en el punto sexto usted ha vuelto a hacer lo mismo

para hablar con absolutamente nadie para intentar llegar a un acuerdo cuando esta iniciativa también es suya y algo tendría que haber puesto usted

y no lo ha hecho en absoluto pero vamos tampoco nosotros considerábamos que era necesario porque el compromiso ya está asumido y está asumido y lo dijo claramente como he dicho

el otro día en el ámbito del reforzamiento de la protección social manifestó que el departamento de trabajo y empleo está llevando a cabo un repaso

con todas las aportaciones que se hicieron por expertos y asociaciones además en dos ocasiones en dos bloques de comparecencia diferentes

además todo lo referente al ingreso mínimo vital recientemente aprobado por el gobierno de españa

texto de borrador que se aprueb que se tramitará como proyecto de ley

mucho la capacidad de actuación de lanbide que debe ser instrumento de activación para el empleo que sin embargo debe atender a personas que no van a reactivarse laboralmente como son los pensionistas esta realidad ya estaba prevista

en la pasada legislatura separando la renta de pensionistas del resto de rentas de garantía de ingresos por ese objetivo precisamente

un reforzamiento de la renta de garantía de ingresos que no una mera reforma

de éxito que sigue siendo el modelo de referencia del resto de españa y que además ha sido un modelo utilizado en navarra y cataluña también para abordar esta reforma y también la vicelehendakari indicó que el punto de partida no puede ser el análisis de las deficiencias sino del modelo de protección que tenemos

perfeccionarlo para mejorar la ley vigente se aprobó hace doce años en el dos mil ocho y después estalló

a unos ingresos mínimos varias cuestiones a mejorar se llevó a cabo la reforma del dos mil once momento en el que

pasa a lanbide y se inició en la pasada legislatura la reforma de la renta de garantía de ingresos para mejorarla

durante aquella crisis pudimos ver que no solo se acogían muchas personas que perdían su empleo a la misma sino que se incrementó mucho el número

en activo que tenían que acudir a ella los llamados trabajadores pobres y que representan el dieciocho por ciento de los perceptores de la renta de garantía de ingresos

laboral existente y manifestó la vicelehendakari la necesidad de romper ese bucle porque esta nueva ley debe garantizar el doble derecho el de los ingresos y la inserción laboral para este último asunto la proposición de ley ya apuntaba por los y el fomento del empleo incluía esa responsabilidad en las propias administraciones públicas

pública y en resumen el departamento de trabajo y empleo señalaba que quiere que la red de protección sea

y laboral porque sea eficaz a la hora de que puedan encontrar un empleo digno estos trabajadores o esas personas que están percibiendo la renta de garantía de ingresos y ese proceso la vicelehendakari

del sistema vasco de empleo y la necesidad de diseñar un nuevo modelo de gobernanza integral para el empleo

entre nacionalistas vascos y socialistas vascos y este modelo sobre el que reflexionar indicaba que será el de las

recualificación y recolocación en definitiva el compromiso muy amplio y es por ello por lo que lo pedido por el grupo proponente como he indicado pues nos parecía que no era necesario llegar a un intento de enmienda transaccional porque ya es un compromiso firme asumido por parte de este gobierno y por otro lado nosotros hubimos también y estoy de acuerdo

de planteamientos de otros grupos como el que ha hecho la señora martínez de vox ha puesto su foco en el control de fraude de la renta de garantía de ingresos en su enmienda a la totalidad siguiendo también el discurso que en las dos anteriores legislaturas ha tenido aquí en esta cámara el grupo popular entonces y ahora popular

en el fraude ustedes consiguieron que toda la cámara nos pusiéramos de acuerdo

xenófobo que estuvo defendiendo el partido popular en la décima legislatura precisamente por eso y eso es una de las razones que impidieron también que en esa décima legislatura

acometer la reforma de la renta de garantía de ingresos precisamente por el discurso que ustedes mantenían en aquel momento continuaré dando más explicaciones en mi segundo turno porque ya se me ha

señora garrido le cito en definitiva la misma iniciativa

usted sabe que suele haber dos comentarios clásicos en esta cámara

en plan despectivo a mí personalmente me parecen interesantes siempre me han parecido interesantes porque cuando llegas aquí empiezas a entender algunas cosas no entonces

vertiente tremendamente interesante a mi juicio pero yo no le voy a acusar de eso eh no hoy no no le voy a acusar de eso a mí me parece un debate muy bien traído hoy ya que considero que este debate engarza

de lo coyuntural que veíamos hace tres puntos ahora toca el debate de lo estructural como decía también el señor

y es tremendamente interesante y necesario sin ninguna duda con dos partes no renta de garantía de ingresos reforzar la protección social y por otra parte transformar el sistema público de empleo lanbide

el parlamento ha tenido muchos debates sobre los dos asuntos y soy plenamente consciente tanto de las fallas de ambos sistemas como de las dificultades de partida por las visiones que tienen los diferentes grupos parlamentarios a mí también me parece un buen punto de partida este veamos

eh el pleno del veintiséis de enero del dos mil diecisiete primero las personas

las personas en aquella interlocución conocía a nerea kortajarena

ya conocía a laura garrido y a gloria sánchez aquel debate era sobre lanbide como ha dicho la señora sánchez

estuvo bien segundo el acuerdo el acuerdo aquel día aquel día acordamos sobre lanbide sesenta y seis a favor nueve

un buen comienzo un buen comienzo tercero la iniciativa como hoy de la señora garrido pero también de la señora guanche era una se acumularon las iniciativas no se olvide de esto eh señora garrido aquella

de las dos en este sentido señora garrido me parece importante ya se lo he dicho que se traiga la iniciativa pero si dentro de unos meses en quince discursos consecutivos nos ha contado sistemáticamente que el partido popular fue el primero en traer esta iniciativa a la cámara entenderá

creo que es entendible en cualquier caso el contenido a ver yo no puedo quiero ser sincero no no puedo renunciar totalmente a mi visión no puedo renunciar totalmente a mi visión

prometer que voy a hacer todo lo posible por acercarme a aquel buen comienzo al texto suyo señora garrido nosotros hemos enmendado en tres puntos pero en gran medida nuestro texto de enmienda entiendo que ha quedado

ampliado y detallado por la presentación de sus líneas generales del departamento sin ninguna duda por eso me gustaría recuperar algunos mensajes

eficacia en la recuperación del empleo y para no dejar a nadie atrás por ello a este departamento a este gobierno le corresponde liderar

de empleo personalizado efectivo que conecte las necesidades de las empresas con las necesidades formativas de los trabajadores y trabajadoras dos reforzar la red de protección social para que nadie que lo necesite se quede sin un recurso pero sobre todo para que cada vez

precisamente hayamos acertado en lo primero en facilitar las oportunidades de empleo el gobierno vasco su departamento trabajo y empleo no va a ocultar nunca las dificultades pero tampoco se van a paralizar por ellas

su determinación y aquí me voy a unir y nuestra determinación es clave este parlamento va a aprobar una ley de garantía de ingresos e inclusión y va a aprobar una nueva ley del sistema vasco de empleo necesidad por tanto de que todos miremos al futuro que compartamos la necesidad de hacer esos cambios además la actual crisis nos lo exige

si cabe debemos actuar y actuar en dos ámbitos y con dos objetivos reforzar la protección social

están repasando tanto la proposición de ley como las aportaciones que realizaron las decenas de expertos y asociaciones que compartieron en que comparecieron en comisión

que conseguimos en su día reducir el número de beneficiarios pero la pandemia ha cambiado la tendencia

la capacidad de actuación de lanbide como nos lo recordaba

sánchez sabemos y nos decía y ahora le voy a citar sailburu

pero sobre todo que ayude a salir del bache tiene razón también en otra cuestión que nos comentaba vamos a tener tiempo para hablarlo y comparto su reflexión previa

como así lo entienden y defienden todas las organizaciones sociales con sus carencias cierto pero sigue siendo un modelo de referencia

de protección porque solo desde ese punto de partida podemos podremos perfeccionar lo que creemos que es una de las

hemos sabido crear en resumen nosotros también queremos que la red de protección sea un auténtico motor de inclusión social y laboral el segundo de los objetivos

y sí coincidimos en que este proceso tiene que ir el que he descrito anteriormente el que usted nos describía tiene que ir acompañado de la transformación del sistema

la ley del sistema vasco empleo tiene que hacer de lanbide la herramienta más potente para la inclusión laboral y la formación de los trabajadores y trabajadoras

de todos los agentes implicados en las políticas de empleo y lanbide debe ser el eje vertebrador no se trata solo de ser eficaces

que también hay que pensar también en quienes están ocupados pero necesitan

hablamos de servicio de atención de intervención personalizados desde la identificación de las demandas futuras de competencias profesionales y empleo nos recordaba la señora

reorientación recualificación y reconciliación perdón

porque efectivamente todas estas personas todas estas personas somos y me incluyo un capital del que euskadi no puede prescindir

baita zuri ere mendia andrea clásicos de ayer y de hoy podía llamarse lo de hoy eta nik egia esan

tanto en su iniciativa dos por uno que nos ha presentado hoy como en su intervención aunque siempre tan sutil como siempre

y se lo voy a decir con todo el cariño del mundo que a usted el tema de lanbide los desempleados las desempleadas el sistema de renta de garantía de ingresos las personas perceptoras las que no lo son

usted aquí trae la iniciativa porque tiene otros intereses

y le apetece hacer detalle de ellos no eta gustatuko litzaidake benetan esatea eztabaida hau

eta honen inguruko kontsentsuak berreskuratzea da guk dugun helburua aspiramos a recuperar la capacidad de innovación en materia de protección que ha tenido la comunidad autónoma vasca y y aprovechar las ventanas de oportunidad que se nos abren

para abordar un nuevo diseño de nuestro sistema de garantía de ingresos y avanciar y avanzar hacia un modelo más universal menos condicionado más normalizado de mayor alcance

porque decía la señora sánchez que no era necesaria la iniciativa de la señora garrido después de la comparecencia de la señora

una enmienda a la totalidad que estuviera alineada con lo que planteó aquí la señora mendia y no lo está y no lo está

en el que se inspiran otros gobiernos que buscan proteger a la ciudadanía y lo es y lo ha sido

y ahora toca parar y reparar porque hay muchísimas cosas que reparar

aluvión del covid teniendo una herramienta que no tenían otras comunidades y que ustedes hayan optado por el sistema de las ayudas en lugar de hacer valer el derecho subjetivo a la garantía de ingresos que tenemos reconocido en este país

que ustedes no hayan hecho una modificación ninguna para poder adaptarlo y hayan optado por un sistema menos garantista porque ahora nos dicen no la protección va a venir de la reforma

un año de tramitación ustedes nos proponían eh partir de la propuesta de reforma que trajeron

cuándo vamos a empezar a proteger a la gente mientras tanto qué hacemos estamos ante una situación bastante gorda

y a mí me gustaría que se aclarara se va a tomar como referencia una propuesta que es lesiva que recorta derechos y que desde luego que no responde a esos objetivos que usted señora mendia nos planteó se va a partir de ahí

en un proceso que ha sido ejemplar las entidades han venido

orain lau urte bezala que nos planteen que uno de los ejes de actuación va a ser también el control de las ayudas

me parecía a mí que con los nuevos aires había algunas pantallas que estarían ya superadas o que por lo menos o por lo menos se iban a disimular

que luego se sorprende la señora sánchez pero es que está en su enmienda y les pediría coherencia y claridad les pediría coherencia y claridad mira

eskerrik asko presidente andrea bueno decían varios portavoces que si es un tema recurrente el raca raca

usted me decía que esta fue sí fue la primera iniciativa que presenté la legislatura anterior

correspondiente y la reflexión correspondiente y efectivamente hubo acuerdo pero es que luego ustedes

después de ese acuerdo es que no hicieron nada y lo que hicieron lo hicieron mal y encima a través no del instrumento que

yo señora martínez le agradezco su aportación con la matización obviamente que le he hecho y como usted bien sabe me imagino que se habrá molestado en leer hemeroteca pues es que llevamos mucho tiempo

obviamente pues no ha hecho lo que debería de haber hecho en esta

las ayudas y el sistema funcione de forma eficaz sea sostenible sea justo y que en el sistema estén las personas que realmente lo necesitan ni más ni menos yo creo que en eso

tan básico ustedes luego lo desdibujan y hacen

partidistas y desde luego que creo que no contribuyen a buscar precisamente ese sistema que nosotros defendemos y en ese sentido pues obviamente sus propuestas y las nuestras difieren sustancialmente

el sistema de protección social de ayudas sociales a través de la modificación de la ley vigente la ley del dos mil once que no sé señora sánchez desde luego cuando yo le oigo ciertos calificativos en esta tribuna que

diga lo que quiera no le pegan ni con su trayectoria ni con su educación

que están fuera de lugar y no sé si le parecería también xenófobo el acuerdo que alcanzamos en el año dos mil once

con ustedes cuando estaba patxi lópez en el gobierno en el que se incrementó

en donde se podía rechazar en la legislación del dos mil ocho hasta tres años

en las ayudas sociales no sé si entonces ese acuerdo le parecía xenófobo no sé si también le parecía xenófobo la rebaja que anunció

en ese momento como portavoz de gobierno reduciendo la cuantía del siete por ciento de la rgi por lo tanto creo que aquí cada uno tiene que saber en que ha estado y sobre todo en el lugar en el que quiere estar y está bien respetar las legítimas posiciones de los distintos partidos

de nuestra democracia señor aiartza ya le he dicho es que ustedes no han cumplido pues son

yo empezaba mi intervención señalando que la consejera artolazabal ya sé que ahora está desligada de la materia sí ya sé ya sé que antes era del departamento de

que no tenga mucha confianza en materia de empleo cuando esta materia la materia de empleo está en manos del partido socialista visto lo visto también permítanos que desde el grupo la coalición partido popluar ciudadanos

la desconfianza pero en cualquier caso yo le deseo suerte señora mendia y sobre todo le deseo suerte y sobre todo bueno pues que podamos ver y se haga realidad esa reforma de la

que tiene que ser pues obviamente también la enmendaremos

señora kortajarena también me ha sorprendido alguna palabra que usted ha dicho porque

desde la diferencia siempre creo que usted se ha caracterizado por ser respetuosa y obviamente aquí

en esta materia las posiciones que ustedes defienden aunque lógicamente no vamos a tener ningún punto de coincidencia y usted lo decía al final de su intervención el gobierno tendrá que elegir claro es que yo creo que ese fue el dilema también la pasada legislatura

en esa circunstancia y en esa coyuntura política era necesario otro grupo

de si se acercaba hacia las posiciones del partido popular de exigencia y de configurar realmente un sistema justo y que las personas y que el objetivo fuera la empleabilidad y que el sistema tuviera una puerta de entrada y una de salida o acercarse hacia otras

son muy distintas a las del partido popular ustedes ahora verán si quieren ensanchar ese acuerdo

está muy clara y no solo por lo que yo hoy y este grupo ha manifestado hoy en esta tribuna sino desde hace mucho tiempo

saben fue así y ustedes fueron por la senda en ese momento que marcó el partido popular aceptando algunas de nuestras reivindicaciones

considera necesario mejorar el control de la gestión de las prestaciones sociales

de documentación a personas de origen extranjero para obtener de manera indebida

repito no lo digo yo lo dice la fiscalía de álava eskerrik asko martínez andrea elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria

y además utilizan ese tipo de noticias simplemente pues para

a ustedes cogen una noticia de este tipo lo hizo anteriormente el partido popular y ahora vienen ustedes a hacer lo mismo y le ponen una lupa

la sociedad y precisamente entre las capas más humildes de la sociedad y juegan con ellos y juegan con ellos ustedes porque el problema

no accede a este tipo de medidas que son un derecho subjetivo

acceder no es el pequeño fraude que pueda haber o el hecho

ha mencionado por lo tanto ustedes lo que hacen es intentar generar

y esa es una actitud clásica y una política clásica del fascismo de toda la vida desde los años treinta eso es así y ustedes siguen

yo sí creo que su iniciativa es genérica y además usted cuando la ha descrito es genérica

de hecho yo me alegro porque si la iniciativa hubiera sido concreta con lo que el partido popular propone sobre estas materias pues

y permítame la expresión le hubiera dado más leña porque su modelo de reforma dista mucho del nuestro porque usted ha dicho una cosa en la que tiene razón

yo coincido lo ha dicho también la señora kortajarena

los partidos que apoyan al gobierno y el gobierno vasco en esta materia tendrá que elegir no porque nosotros le pidamos

entre compañeros de viaje no sino porque lo que el partido popular propone en estas materias y lo que otros grupos proponemos en estas materias es muy distante

en sentido contrario y por eso nosotros lo que vamos a pedir a la consejera vamos a esperar a ver cuáles son los planteamientos concretos tanto en cuanto a lanbide como

en la inclusión social vamos a esperar a ver qué es lo que proponen pero nosotros el mensaje que les queremos trasladar aprovechando este debate que se ha traído a la cámara es que lo que había encima de la mesa al final de la anterior legislatura a nosotros

fuimos muy contundentes nos parece que era un paso atrás

y si hay un cambio nosotros no vamos a utilizarlo para hacer sangre en cuanto a que el gobierno rectifique

un cambio para que estas políticas sean más útiles

viva mejor en euskadi eso es lo que nosotros le pedimos en ese sentido aprovechando este debate besterik ez

gracias exclusivamente al partido popular pero desde luego señora garrido yo le garantizo que tengo mucha educación y le agradezco que se haya referido

pero gracias a esa trayectoria también tengo memoria y hay hemeroteca y usted ha dicho que durante seis años

pero por qué no se ha hecho esa reforma si ustedes tienen mucho pecado en que no se haya efectuado esa reforma vamos a ver que todos conocemos la historia

aquí estaba su compañero el señor maroto que precisamente no lo digo yo lo dijimos yo creo que muchos miembros de esta cámara el señor maroto hizo un discurso homófobo y racista sobre este tema

que se pudiera tener un discurso sereno para poder llevar a cabo en aquella legislatura la reforma de la renta de garantía de ingresos y eso es una realidad no es un insulto es una realidad de lo que pasó y a partir de ahí llegamos a la once legislatura

avanzar en la reforma de la renta de garantía de ingresos consideramos el grupo nacionalista vasco y el grupo socialista que trayéndolo como proposición de ley podíamos sacar y avanzar y adelantar discurso y separarlo de elecciones que iban a venir en el dos mil diecinueve eso es lo que intentamos un año estuvimos intentando negociar un

un año no se consiguió y ustedes no presentaron ni propuesta en ese año

sobre una mesa no se llegó a un acuerdo junio

vamos a devolverlo al gobierno vasco para que siga su tramitación como proyecto de ley qué hacen ustedes ay vienen aquí y se abstienen y se queda otra vez aquí empiezan las comparecencias

para todo el tema de la proposición de ley para que se tramite aquí y ustedes qué dicen otra vez en el discurso

haber votado en contra y haberla devuelto en aquel momento en el gobierno no se abstienen pero vuelven a decir

es que han sido muy incoherentes durante todo esto y desde luego no es gracias a ustedes

es todo lo contrario afortunadamente en esta legislatura existe una mayoría diferente y sumamos mayoría

trabajar y sacar una reforma de la renta de garantía de ingresos eso desde luego no va a impedir intentar llegar a acuerdos con el resto porque hemos defendido aquí

que una reforma de este tipo tiene que salir con el máximo consenso posible y se va a trabajar ese consenso

y cuando venga lo intentaremos pero no intente

porque en esto el partido popular tiene todo el pecado del mundo de que estemos en la situación en la que estamos ahora mismo

conseguiremos la reforma y la vicelehendakari y la consejera de trabajo y empleo traerán la reforma y el proyecto modificado

las mejoras que se van a introducir y con el ingreso mínimo vital dentro y conseguiremos seguro llegar a un consenso para poderlo sacar dentro de esta legislatura

lehenik eta behin esatea señora garrido no pensaba que pito era para tanto

que era un palabro para tanto pero en todo caso me disculpo no era mi intención ofenderla y se lo he dicho desde el cariño pero es que considero que a ustedes todo esto les importa un pito y que tienen otros intereses tampoco quiero ofender a nadie tampoco quiero ofender a nadie con esto que voy a decir y voy a intentar decirlo medido pero es que también estoy hasta el moño

de que se culpabilice constantemente a las personas más pobres de las situaciones que viven se haga de manera directa o se haga de manera sutil

porque la renta de garantía de ingresos no tiene un problema de fraude de las personas perceptores tiene muchos problemas vinculados a la gestión

muchos muchos pero creo que

que tiene la renta de garantía de ingresos así que lo digo otra vez estoy hasta el moño de que se culpabilice a las personas de las situaciones de las experiencias vitales de pobreza que están viviendo y creo que hay que ser además muy claro para euskal herria bildu

en la enmienda de los grupos que sostenían el gobierno aparecía el tema del control de las ayudas hacían además ustedes cómplices a las entidades del tercer sector

pero creo que es un tema lo suficientemente importante que tiene un impacto en la vida de las personas lo suficientemente importante

una situación lo suficientemente complicada para que nos dejemos ya de estas historias y espero no haber ofendido a nadie pero haber sido clarita por eso a ustedes mismos les pido la misma claridad y coherencia

gauza bat esaten da asmo batzuk agertzen dira pero luego casualmente hay momentos en los que se les ve la patita se les ve la patita y resulta que ustedes tienen algunas coincidencias con los grupos proponentes con el grupo proponente porque las señora sánchez mencionaba al señor maroto

y usted la defendió con vehemencia

entonces un poquito de coherencia y de claridad

muy interesante lo vamos a tener en cuenta proposamen bat bera ere

aquella propuesta de ley con la que la única que estaba cómoda era la señora garrido que casualmente era la única que había quedado fuera del acuerdo